el parlamento vasco invita a la ciudadanía a adoptar compromisos personales y colectivos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres

que tenemos una responsabilidad crucial en su erradicación a que desarrollemos planes integrales dotados de los recursos necesarios para lograr su definitiva desaparición de tal modo que no se vuelva a producir ningún acto de violencia contra las mujeres y mucho menos asesinatos como el que ha costado la vida

compartir con ustedes la idoneidad de la presente proposición de ley la necesidad

proposición de ley que lo que pretende fundamentalmente además de los artículos señalados y objeto de modificación

para garantizar el buen funcionamiento de nuestra iba a decir economía que también el buen funcionamiento

en general de control venimos tiempo discutiendo en esta cámara y fuera de ella pero fundamentalmente en esta cámara a través de la tramitación

sobre la necesidad de seguir abundando en criterios de transparencia de dotar a nuestras herramientas

herramientas legislativas de elementos de eficacia de independencia por lo tanto también de cómo hacemos para que los órganos de control de los que nos dotamos sean cada vez más independientes o garanticemos a través de las modificaciones pertinentes esa independencia también hemos

cómo podemos hacer para achicar los espacios de esas llamadas puertas giratorias en definitiva de lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo es de cómo hacemos para dotar a nuestra legislación de herramientas que la perfeccionen que a través de esa perfección

agrandar y mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones

y en definitiva mejorar nuestro sistema y mejorar

de gobierno en ese sentido la proposición de ley que el partido popular

su aprobación a la tramitación tiene dos o tres cuestiones fundamentales sobre las que quiero compartir con ustedes una muy breve reflexión no creo que todos hayan tenido la oportunidad de leerlos en detalle con lo cual me parece oportuno traerlo así de esta manera

tres cuatro aspectos fundamentales el primero de ellos

el titular de la presidencia de la autoridad vasca de la competencia será nombrado por el gobierno vasco tal y como reza la ley por un periodo de seis años sin posibilidad de reelección nosotros creemos que esa imposibilidad de ser reelegido garantiza y profundiza también en la autonomía y la independencia

de la presidencia del órgano de la autoridad vasca de la competencia y que además será elegido entre juristas economistas

con más de doce años de ejercicio profesional en el ámbito de de dicha autoridad otro de los aspectos fundamentales que defendemos y que queremos introducir es que la personas propuesta por el gobierno deberá ser elegida

previa comparecencia después de esa propuesta del gobierno ante la comisión correspondiente del parlamento vasco con arreglo a nuestro reglamento dice también nuestra modificación que el parlamento vasco a través de su comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta

podrá vetar el nombramiento del candidato propuesta en el plazo de un mes natural etcétera etcétera nos parece fundamental

pueda tener también no solo voz sino un criterio y una opinión determinante a la hora del nombramiento de la presidencia de la autoridad vasca de la competencia y a buen seguro esto permitirá también que los criterios a la hora de elegir y de señalar y de designar

sean más exhaustivos porque va a estar sometido también al buen criterio

de esta cámara asimismo

de la ley vigente que quedaría redactado de la siguiente manera el titular de la presidencia de la autoridad vasca de la competencia estará sujeto además

así como abstención y recusación en su caso establecidas para los jueces será en todo caso incompatible con el ejercicio de su profesión o de cualquier otra actividad remunerada o no se endurece como ustedes podrán comprobar

los criterios para poder presidir el órgano aludido asimismo

en el apartada cuatro del artículo siete planteamos que la persona titular de la presidencia

y absoluta asimismo no podrá ser titular de la presidencia

ninguna persona que directa o indirectamente

haya comparecido ante la propia autoridad de la competencia en calidad de persona interesada o representante de alguna persona interesada siguiendo con esta línea argumental de reforzamiento de los criterios de independencia y de ecuanimidad también planteamos en este caso creando un apartado cuatro bis al artículo siete

de la autoridad vasca de la competencia aquella persona que en los seis años anteriores haya estado comprendida en alguno de los siguientes supuestos que haya sido miembro de esta cámara parlamentario vasco diputado en el congreso de los diputados senador

u organizaciones representativas de trabajadores o empresarios

o cualquier cargo político administrativo del estado de comunidades autónomas consejero del gobierno vasco procuradores apoderados en juntas generales es decir las puertas giratorias

que hasta la fecha han tenido no quiero abrumarles más ni aburrirles porque los criterios y el planteamiento por breve es contundente y es conocido por cualquiera que se asome al texto que tienen ustedes en sus manos en cualquier caso

a la tramitación de la presente proposición de ley sí quiero hacerles dos consideraciones

alega que no existe y lo dice de una manera taxativa y cito literalmente que no existe antecedente

al veto propuesto por el partido popular y que se tramitaría a través de esta cámara bueno no es cierto no es cierto porque

tres barra dos mil trece de cuatro de junio de creación de la comisión nacional de los mercados y la competencia regula expresamente el veto del congreso de los diputados al nombramiento de un candidato a presidente vicepresidente y miembro del congreso existen antecedentes jurídicos no solo antecedentes sino presentes jurídicos

se pronuncia sobre un nombramiento sobre una propuesta de nombramiento del propio gobierno en este caso de españa y

y que lo que sí tiene que hacer el gobierno de españa que es tramitar y someter a consideración del congreso de los diputados un nombramiento aquí el gobierno vasco no lo tiene que hacer y este parlamento queda excluido de esa deliberación

por lo tanto quedaría desmontado este argumento utilizado por el gobierno también el criterio del gobierno vasco en su oposición se fundamenta en que la independencia imparcialidad y objetividad y también cito literalmente queda preservada con la actual norma vigente

renovables bueno son opiniones y como todas cada uno tiene la suya y este es un criterio muy subjetivo nosotros creemos que la imposibilidad de ser renovado

no tiene miedo a que determinadas decisiones puedan influir en su renovación o no y por lo tanto teniendo una fecha de caducidad a su presidencia se puede sentir objetivamente

a la hora de efectuar su trabajo y otro de los criterios

si es que los anteriores no lo son suficientemente es el argumento de que cuando se tramitó el actual ley vigente la ley uno barra dos mil doce de dos de febrero

bueno muchos de ustedes saben que las leyes no son inmutables y que se pueden reformar y tramitar tramitar su reforma

las circunstancias políticas sociales y de opinión pública eran otras y que los requisitos que se exigían para acceder a los órganos de control eran probablemente más laxos han pasado al menos cinco años pero en esos cinco años han pasado muchas cosas y lo mismo que debatimos en esta cámara en el pasado sobre el tribunal de cuentas

sobre la ley de transparencia e introducir requisitos de control a los poderes públicos esta también es una de las herramientas fundamentales de control

de las empresas privadas y nos parece fundamental e importantísimo introducir estos criterios estos son los argumentos fundamentales

su aprobación para que podamos debatir en esta cámara estas consideraciones estas propuestas que hoy le sometemos pero

por los cuales se rige el tribunal descrito muchas gracias

los socialistas vascos salimos en este turno en contra de la proposición planteada por el partido popular por varias razones primero porque la ley uno barra dos mil doce dos de febrero de la autoridad vasca de la competencia aprobada en su día por este parlamento

cuya actividad se ajusta al derecho público y es un organismo autónomo de carácter administrativo y al querer dotarle de autonomía orgánica y funcional respecto a la administración a la que se adscribe este organismo se integra como una administración independiente

una actividad integrada en la órbita del poder ejecutivo la característica común en las administraciones independientes

en el cumplimiento de sus fines es decir que implica la exclusión de las directrices gubernativas

ante la administración gubernativa así como las facultades de revisión de oficio

por esta esa independencia alcanza además a los elementos personales de la organización a los cuales aun siendo nombrados por el ejecutivo se les garantiza

se busca además en estas administraciones independientes una sintonía entre el mandato de los miembros de estas organizaciones y el del gobierno que les nombra a través de los mandatos

en nuestro caso la autoridad vasca de la competencia tiene seis años de vigencia antes de ser renovado

estamos ante un organismo que puede considerarse administración independiente dado que desarrolla su actividad con autonomía orgánica y funcional y ejerce sus funciones con plena independencia del gobierno vasco y también de los agentes económicos

que produzcan indefensión o perjuicio irreparable son recurribles ante el consejo vasco de la competencia y no ante el departamento de hacienda al cual se adscribe ese organismo

o del consejo solo cabe interponer recurso

puesto que finalizan la vía administrativa los titulares de la presidencia

y de la dirección de investigación son nombrados por un periodo de seis años cesando en el cargo solo por los motivos que expresamente se determinan en la ley

tiene la consideración de alto cargo y están sujetos al régimen de incompatibilidades de los mismos

es incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo o actividad que pueda comprometer su independencia y tiene un régimen de incompatibilidades específico que alcanza los dos años anteriores a su nombramiento y los dos años posteriores a su cese

esta resulta limitada proporcionada y respetuosa con los principios que deben regir su actuación

se prevé únicamente la participación del departamento competente en el establecimiento de las directrices de la autoridad correspondiendo a la presidencia

aprobar los planes de actuación en los que se definen objetivos y prioridades mientras que el control de la eficacia y eficiencia de su actividad por el departamento de hacienda

para evitar precisamente un exceso de celo por tanto habiendo dejado clara la actuación con independencia de criterio de la autoridad vasca de la competencia y su autonomía orgánica y funcional los socialistas manifestamos nuestro criterio contrario también a esta proposición de ley que hoy se nos trae

no existe en el ordenamiento jurídico nombramientos de cargo público

por parte del parlamento vasco ni siquiera cuando se trata de nombramientos que realice el propio parlamento vasco en tercer lugar la ley

tuvo un amplio consenso en esta cámara y contó también con el pleno apoyo del partido popular

el partido popular los requisitos exigidos para el nombramiento de las personas titulares de sus órganos para garantizar su capacidad su competencia su independencia

por un periodo de seis años renovable entre juristas economistas y otros profesionales de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de actuación de la autoridad y está sometido al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la administración

y ejercerá sus funciones actuando con independencia plena y absoluta en cuarto lugar cuando discutimos el proyecto de ley

se reservaron por los grupos parlamentarios algunas enmiendas para la discusión plenaria en esta cámara entre esas enmiendas estaba la del requisito de antigüedad de diez años

votó junto al grupo socialista en contra de esta enmienda por entonces considerábamos

en el ámbito de actuación de la autoridad era mérito suficiente y de rigor para que se ejerciera dicho cargo no entendemos por tanto

con el grupo nacionalistas vascos consensuamos en su momento en el año dos mil doce y aceptamos y transamos

que habían presentado tan solo quedaron tres para la discusión plenaria y entre esas estaba el tema de los diez años de antigüedad para la presidencia

reservó una serie de enmiendas para el pleno aunque se asumieron también por parte de la ponencia un importante número de ellas el propio tribunal vasco de la competencia de entonces hizo una serie de aportaciones que fueron en algunos casos también incorporadas al proyecto de ley y en otros casos no se tuvieron en cuenta porque se entendía que la propia ley

pretendía plantear sea como fuere aquella ley tuvo un importante consenso un amplio consenso en esta cámara hace cinco años

y no se ha dado hasta la fecha ningún caso de puertas giratorias con este organismo autónomo como señala el partido popular a través de su proposición en algo que quiere evitar yo creo que el partido popular está poniendo la venda antes que la herida

porque cada vez que ha venido la autoridad vasca de la competencia a realizar sus memorias anuales compareciendo en la comisión de hacienda nunca se ha dado ningún problema en cuanto a la independencia la objetividad de criterio que haya podido tener este organismo hemos tenido ocasión en este parlamento de analizar y debatir

muchos en los asuntos de la contratación por ejemplo de los servicios de comedores públicos que realizaba el gobierno vasco también se analizó el informe que realizó la autoridad vasca de la competencia respecto a la ley de turismo exhaustivo informe respecto a ese proyecto de ley por lo tanto no eran precisamente ambos temas favorables para el gobierno desde el punto de vista del informe que realizaba la autoridad vasca de la competencia informe que realizaron con total independencia y con total objetividad de criterio

pretendió en ningún momento ninguna modificación a aquellos informes por lo tanto no hubo ningún atisbo de injerencia ni política

ni de este propio parlamento como digo no hubo ningún atisbo de injerencia en esos informes o para que la autoridad

la autoridad vasca de la competencia no tiene el mismo tratamiento que el tribunal vasco de cuentas públicas no es lo mismo no está determinado de igual manera por tanto entendemos que su proposición la que hicieron en su momento y

respecto a la modificación del tribunal vasco de cuentas públicas no viene al caso para la autoridad vasca de la competencia a nuestro modo de ver los socialistas vascos creemos que a pesar de los beneficios derivados para el conjunto de la sociedad

en determinadas ocasiones los intereses particulares de algunos agentes económicos pueden no coincidir con los principios

y los incentivos para llevar a cabo prácticas restrictivas de la misma pueden ser importante

confiamos en que la intervención de la autoridad vasca de la competencia en esos casos es cuando se hace realmente necesaria para garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados y que sus beneficios alcancen al conjunto de la sociedad

a la autoridad vasca de la competencia manteniendo la ley como está sin modificarla cuando es una ley plenamente garantista como digo para el mantenimiento de los criterios de objetividad

en ese sentido he de recordar

que la ley que se pretende modificar y que creó la autoridad vasca de la competencia fue aprobada con ese importante respaldo parlamentario incluido el del propio señor sémper

ni usted señor sémper ni el portavoz de su grupo en esta materia señor damborenea pusieran en duda los requisitos exigidos en el nombramiento de las personas

no hace falta refrescar la memoria del señor sémper porque él mismo lo ha puesto de manifiesto pero tengo que recordar que la ley en cuestión no procede del paleolítico no data del paleolítico sino que

es seguramente siempre deseable y bueno revisar las leyes aprobadas por esta cámara pero estará conmigo que para ello es conveniente

mantentzen du agintaritzak dicho lo cual es por ello que se nos hace extraño que el señor sémper venga ahora a sembrar dudas acerca de la avc acerca de la capacidad acerca de la competencia acerca de la independencia o de la imparcialidad dicho órgano y de las personas titulares de los mismos cuando en estos más de cinco años de existencia nunca se ha planteado ningún reproche acerca de estas cuestiones

de las personas titulares de los órganos de la autoridad vasca de la competencia queda preservada

al establecer su nombramiento por un periodo superior al de la legislatura y solo pudiendo cesar en sus funciones por causas tasadas en la propia ley todo lo antedicho debería ser explicación suficiente para justificar nuestra postura contraria a la toma en consideración de esta proposición de ley

hay cuestiones que el proponente ignora y que no son nada baladíes por ejemplo la propia naturaleza del órgano ya que la autoridad vasca de la competencia como ha recordado la señora corcuera es un organismo autónomo administrativo y forma parte del sector público de la comunidad autónoma de euskadi y las personas titulares de sus órganos tienen la consideración de alto cargo cuyo nombramiento compete única y exclusivamente al gobierno vasco esto es

como he dicho antes se reproduce la estructura de las principales autoridades de la competencia tanto a nivel estatal como internacional si abogamos de verdad por la separación de poderes es más que obvio que cada poder tiene su marco de acción por lo que

por parte de este parlamento tal posibilidad no existe ni aun cuando se trata de nombramientos que corresponde realizar al propio parlamento vasco en ese sentido

con otras que el mismo grupo el grupo popular ha traído a la cámara y que con una puesta en escena muy similar han

estoy pensando en el tribunal vasco de cuentas públicas pero no podemos obviar que ese órgano depende directamente de este parlamento que es quien lo nombra

situación bien diferente a la que tenemos ahora entre manos esta proposición de ley no propone otro modelo de autoridad de la competencia sino que se centra

nada se dice en la proposición acerca de la dependencia de la autoridad vasca de la competencia u otras cuestiones relacionadas por todo lo dicho nuestro grupo votará en contra de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el grupo popular eskerrik asko

sí intentaré responder bueno intentaré no voy a responder a la señora corcuera y al señor latxaga al portavoz del partido nacionalista vasco y del partido socialista

son lo mismo entonces y los argumentos han sido exactamente lo mismo

en un argumento utilizado también por su compañero

recordaba nos recordaba a todos iluminándonos que estamos hablando de un órgano que pertenece a lo que viene a ser la administración independiente que goza de independencia gobernativa que ejerce sus funciones con independencia al gobierno y esto es un argumento también utilizado por el señor portavoz del partido nacionalista vasco oiga lo nombra el partido nacionalista vasco en este caso lo nombra el gobierno vasco

especialmente notable porque si ese argumento esgrimido por usted lo hiciéramos extenso a todo tampoco podríamos pedir la reprobación o criticar a una consejera

a esta cámara a que compareciera un director general un

un viceconsejero no podríamos llamarle para que compareciera a una comisión porque como ha sido nombrado por el ejecutivo qué hace el legislativo metiéndose

mire yo creo que es importante que establezcamos una base nosotros aquí no somos unos convidados de piedra hemos sido elegidos por los ciudadanos para legislar y para controlar la acción del gobierno y esto es algo muy serio

reformando numerosas herramientas de autogobierno para perfeccionarlas y mejorarlas para mejorar la transparencia y su eficacia en el control de los órganos de poder y de gobierno para eso también estamos elegidos

y lo que estamos planteando es que si el gobierno vasco tiene entre sus atribuciones

de la autoridad vasca de la competencia esta cámara legislativa ante un nombramiento del ejecutivo puede pedir

qué me está usted hablando de separación de poderes esta es la separación de poderes

a usted no le llama la atención poderosamente la atención

diga que no existe ningún antecedente similar en el mundo oiga que el congreso de los diputados tiene que dar el ok al nombramiento del gobierno de españa del presidente de la autoridad de la competencia

y aquí resulta que no ustedes nos quieren hurtar ustedes junto con sus socios del partido socialista y no sé si el resto de grupos le van a apoyar este veto esto sí que es un veto

en el congreso en este caso de los diputados y aquí nosotros no vamos poder hacerlo

esto oiga esto no nos lo hemos inventado es que ustedes no lo enmendaron

este apartado en el que se sometía el que se sometía a buen criterio del congreso de los diputados en el nombramiento del gobierno

votamos a favor de la ley claro la ley está muy bien la ley es razonable

es que no vamos a debatir también sobre la ley del tribunal vasco de cuentas porque creemos que hay que mejorarla y claro que han pasado cosas señora corcuera

en los usos y costumbres de la política vasca claro es que no nos fiamos es que tenemos que mejorar estos órganos de control porque hemos visto que no nos podemos fiar

claro es que en estos cinco años han pasado muchas cosas pero ha habido una notable oiga es que ha habido un diputado general que ha sido nombrado presidente del tribunal de cuentas

sin despeinarse le han nombrado presidente del tribunal de cuentas a bombo y platillo a alguien que todavía seguía siendo diputado general

y nos vienen aquí a decir oiga ustedes de qué se asustan pero esto que es de ponerse la venda antes oiga la venda no ya tenemos herida ya sabemos cómo funcionan en algunas ocasiones ustedes y lo que queremos

efectivamente nos ha descubierto es imposibilitar que esto vuelva a suceder efectivamente y por eso también tramitamos una modificación de la ley del tribunal vasco de cuentas porque no queríamos que volviera a suceder

y ahora queremos queremos reforzar también esta ley porque es una ley que se aprueba en esta cámara porque es una ley que permite al gobierno

y porque creemos que por lo tanto esta cámara también puede fiscalizar y puede vetar determinados nombramientos y quién nos dice que mañana el gobierno de turno no va a nombrar a otro diputado general en ejercicio o exdiputado general presidente de la autoridad de la competencia por qué no

que sometemos a su consideración al menos a la consideración de los grupos de la oposición y esto que el gobierno no está dispuesto a introducir estos elementos de control y de transparencia y de mejora de nuestro sistema es que no nos vuelva a suceder oiga abramos un debate

y es que hay gobiernos en este caso el vasco que es capaz de hacer determinadas cosas a nuestra cara y creemos que esta modificación de la ley a ustedes también les va a venir bien

aprobando estos criterios a lo mejor no tengan que volver a pasar la vergüenza que pasaron cuando nombraron a un diputado general

del tribunal vasco de cuentas públicas muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

señor sémper ha comenzado usted su alocución diciendo que presentaba esta proposición por la necesidad de abrir un debate para garantizar el buen funcionamiento de nuestros órganos de control

en los criterios de transparencia e independencia y además de objetividad y porque había que achicar espacios de puertas giratorias bueno primer punto necesidad de abrir un debate para garantizar el funcionamiento de nuestros órganos de control la autoridad vasca de la competencia no es ningún órgano de control

que lo que trata es de la promoción y defensa de la competencia no es el tribunal vasco de cuentas públicas que es otra cosa que se elige de otra manera en la cual interviene el parlamento es diferente totalmente diferente así que

a día de hoy como le decía lo histórico los que pasamos cinco años oyendo las memorias y los informes

que no hace falta esas modificaciones que el partido popular está proponiendo en segundo lugar porque cree usted necesario abundar en los criterios transparencia independencia y objetividad no hace falta abundar en esos criterios se cumplen a cien por ciento en el caso de la autoridad vasca de la competencia

con dos asuntos que implicaban al gobierno y a este parlamento la ley de turismo y la contratación de los comedores escolares

públicos ambos informes eran importantes iban contra lo que se estaba haciendo por parte del gobierno y no ocurrió nada con esos informes se expresaron nadie tuvo ninguna ni realizo ninguna injerencia en ninguno de ellos por lo tanto criterios de transparencia

defendidos al cien por ciento por este parlamento achicar espacios de puertas giratorias bueno

los socialistas apoyamos la modificación de dicho organismo y en cuanto a mejorar nuestro sistema y herramientas de gobierno

de un buen funcionamiento de nuestro sistema de promoción y defensa de la autoridad vasca de la competencia

de dos de febrero de creación de dicho organismo porque en definitiva lo que nos ha traído aquí no es entiendo yo un afán

de desarrollo y que no ha tenido ni un solo de injerencia por parte ni del gobierno ni del parlamento vasco a través de la comisión de hacienda ni un solo caso nada más y muchas gracias

dice que las leyes no son inamovibles

como digo porque parece ser que han mantenido un discurso

bueno pero al hilo de esta cuestión no parece casual oyéndole al señor sémper y

elegido para presentar esta iniciativa sea casual sino más bien parece que trae causa de la marcha del anterior presidenta de la avc y parece ser que lo que pretende el señor sémper por lo menos a mí me queda bastante claro es

una guerra preventiva en la cual el ataque preventivo lo que pretende es condicionar los movimientos futuros de todos los agentes implicados

ya que el zadorra pasa por vitoria pues manchar un poquito el buen nombre de la avc sus órganos también me llama la atención el argumento tanto en el escrito como ahora mismo

del señor sémper acerca de las puertas giratorias no porque las puertas giratorias es una expresión popularizada por podemos

para ir precisamente en su contra para ir precisamente en su contra y especialmente en su contra

o qué es exactamente lo que le pasa pero parece ser que compra aparentemente el señor sémper compra el argumento

de podemos me parece curioso y digo que lo compra aparentemente porque lo trae a esta cámara trae esa proposición de ley a esta cámara cuando en esta cámara tiene escasas posibilidades de éxito

de la ejecutiva central de su partido podía hacer apostolado entre todos los responsables autonómicos

y podía hablar con los diferentes responsables autonómicos porque la mayor parte de las agencias de la competencia

se rigen por parámetros muy similares a los de la agencia vasca de la competencia

y luego también me llama la atención que el partido popular

algunas que otras cuestiones un partido popular que elevando un poco la mirada y yendo al tribunal constitucional tan de actualidad estos días

intérprete de la constitución y garante de los derechos y libertades de los ciudadanos ha tenido y tiene entre sus miembros personas

algún que otro presidente del partido popular con lo cual me llama muchísimo la atención que usted se meta en estos berenjenales y

mire señor sémper esto lo que usted está haciendo hoy aquí tiene nombre propio en el diccionario de la real academia de la lengua

porque está muy bien venir aquí subir a esta tribuna

que no es lo mismo predicar que dar trigo pues usted sube aquí a este púlpito predica solo predica mientras que el partido nacionalista vasco ha estado repartiendo trigo como para llenar de harina todas las panaderías de euskadi eskerrik asko

que esta cámara aborda la cuestión sobre la forma en que se eligen los miembros de una determinada institución y en concreto sobre si las condiciones

pueden afectar a la neutralidad e independencia necesarias para el cumplimiento de las funciones que dichos órganos

tienen encomendadas tampoco es la primera vez que el partido popular se presenta en ese sentido como adalid y defensor a ultranza

y de la necesidad tal y como dicen de una mayor independencia imparcialidad y objetividad para evitar las conocidas puertas giratorias que tendría guasa la cosa señor sémper si no fuera por la conocida trayectoria de su partido

rato bankia telefónica santander entre otras

cinco personas tiene guasa la cosa señor sémper y señor latxaga también podríamos hablar de las de su partido no podemos olvidar además que tampoco es la primera vez que desde nuestro grupo parlamentario nos cuestionamos o solo

si esta iniciativa es suficiente e igualmente desde elkarrekin podemos creemos que una vez más el partido popular se queda muy corto en su formulación por lo que también nos preguntamos si este tipo de iniciativas son tan solo una táctica para ocultar su responsable comportamiento tanto

como en otras a las que desgraciadamente estos días estamos asistiendo el pasado quince de diciembre decíamos que una parte importante de la sociedad vasca ya no pone la mano en el fuego por sus instituciones

así mismo decíamos que era preciso un acuerdo de país para que desde el ámbito político y administrativo todas las instituciones y sus cargos

de las reglas más robustas creíbles y avanzadas con el doble objetivo de que la ciudadanía recupere por una parte su confianza en las administraciones

en su conjunto avance de forma decidida en la defensa del interés público y del bien común

se ha abstenido en esta iniciativa parlamentaria ya que entendemos que la proposición de ley que presenta el grupo del partido popular

para cumplir con los retos que la autoridad vasca de la competencia debe afrontar de cara al futuro ni responde a una necesaria profunda e integral reforma del sistema en su conjunto para afrontar las puertas giratorias y

tenemos la convicción de que una vez más desaprovechamos la ocasión de entrar en una reforma de mayor profundidad porque en el fondo

la necesidad imperiosa de un lavado de cara del partido al que usted señor sémper pertenece en definitiva señores

haciéndose pasar por lo que no son eskerrik asko

y creo que hoy nos va a tocar ser a los de euskal herria bildu pues el punto discordante de todo el debate no

que propone el partido popular al contrario sino porque el debate puede y de hecho debe ir más allá y le voy a coger la palabra al señor sémper que ha dicho que vamos a tener que abrir un debate

no se puede permitir que tenga una dirección política los mecanismos de control órganos públicos de hecho son fundamentales las puertas giratorias yo creo que aquí muchos y muchas deberían tenerlo en cuenta pero lo que no podemos compartir es el

que antepone la competencia como tal por encima de todo de manera extrema además incluso por encima de derechos fundamentales como pueden ser los sociales los derechos laborales incluso medioambientales

un órgano que antepone como misión la llamada libre competencia a las personas

no puede ser garante de las personas desde eh bildu planteamos un debate serio y profundo con las personas y sus derechos como principales protagonistas porque dentro de un mundo competitivo

baina gure ustetan helburua sozial bat ez du betetzen nosotros y nosotras entendemos que las personas consumidoras tienen derechos y que desde luego hay que protegerlos por encima de todo bien pero otro modelo es posible y es por eso por lo que ponemos en duda la función y la estrategia de la autoridad vasca de la competencia

lo dicho cojo la palabra al señor semper y abriremos el debate

en ese camino desde luego nos vamos a encontrar y en el debate nos vamos a encontrar pero vamos a anteponer siempre los derechos fundamentales de las personas

yo no sé si vamos a arreglar el mundo aquí con esta propuesta o no pero creo que teníamos derecho en julio a actuar y a debatir con la urgencia que la situación requería

muy feo decirles a los trabajadores y trabajadoras de estas empresas en julio que el debate sobre su situación no corría ninguna urgencia

les podremos mandar las resoluciones de este debate a su casa para que la pongan

que recibieron en agosto eta harira joanda voy a empezar haciendo referencia a una frase a una pregunta del lehendakari que me lleva rondando

al hilo del conflicto de la situación de la naval el señor lehendakari se planteó y se preguntó en público cómo es posible que una empresa con carga de trabajo esté en esta situación y yo voy a tomarle esa pregunta y se la voy a reformular aunque hoy no está aquí presente y es una pena porque me voy a dirigir a él dada la gravedad del tema que estamos tratando en varias ocasiones yo lo que me pregunto es cómo es posible que un señor lehendakari no sea consciente de la situación crítica a la que estaba abocada la naval

desconozca que una de las principales empresas industriales de este país está

de alarma desde hace años cómo es posible que se sorprenda al señor lehendakari no le toca preguntar le toca responder

de la importancia para su entorno socioeconómico un astillero que es el más grande del país y el más grande a nivel privado de todo el estado que lleva desde el año dos mil catorce dándose la voz de alerta por parte de sus trabajadores y trabajadoras sobre la mala gestión que en el año dos mil dieciséis

por parte del comité de empresa para alertar de lo que se venía encima cómo es posible que cuando se levanta el cartel de crisis el lehendakari se pregunte cómo es posible y no solo no se ha visto venir sino que una vez que esa crisis ha estallado se ha actuado con improvisación

se ha actuado con una voluntad y con un discurso cambiante no hay todavía una posición clara sobre la constitución de la mesa tripartita que han solicitado los trabajadores o sobre la participación pública no hay un informe jurídico

de aportación de capital público a la empresa y me he centrado un poquitín en esta cuestión de la naval no solo porque está

del gobierno vasco ante la política industrial y ante la serie de crisis que estamos padeciendo

empresas encomendadas a muy malos gestores sobre las cuales ya existía señal de alarma desde hace mucho tiempo a las cuales no se les ha sabido dar una respuesta institucional a tiempo para poder hacer frente a esa problemática

en la cual también se ha comentado en esta cámara pero creo que es sumamente significativo la respuesta del gobierno vasco fue la espantada vender sus acciones

como que siendo el gobierno vasco dueño de una parte de una empresa de esa empresa

que no pagaba la electricidad y a la que le llegaron a cortar la luz una empresa que era de todos y todas y que no pagaba la luz

no vamos a entrar en la casuística empresa por empresa porque no tenemos tiempo para ello pero sí queremos decir que con todo este conjunto de situaciones podemos

un síntoma muy claro de un problema que tenemos en este país y que es una crisis

y no digo una crisis industrial generalizada porque no hace falta caer en el catastrofismo ni exagerar entendemos que en la

hay situaciones contradictorias y que hay sectores en los cuales las cosas van aceptablemente bien

se está tirando aumenta la demanda hay empresas también que han hecho bien las cosas y por tanto no estamos diciendo que nos encontremos ante el apocalipsis no hay una crisis generalizada

porque no prevé las situaciones de dificultades en las que muchas empresas están

porque no acompaña de la forma de vida a las empresas una vez que estallan estas situaciones de crisis porque no tiene instrumentos definidos para resolver

y sobre todo porque no lidera por inhibición conscientemente elegida

no solo evitar en el futuro este tipo de crisis aunque es imposible llegar a un momento en el que no haya ninguna crisis evidentemente siempre habrá situaciones en que algunas empresas puedan cerrar pero estamos hablando

la viabilidad y la posibilidad de salir adelante y es verdad que venimos de una crisis importante a nivel global que en otros países ha tenido fundamentalmente una dimensión de crisis quizás en el ámbito inmobiliario en el ámbito financiero y que aquí nos ha impactado de forma muy específica en el sector industrial hemos perdido a raíz de la crisis iniciada en dos mil ocho una buena parte

en este sector y es cierto que tal y como decía el empuje exterior el cambio de ciclo económico están haciendo que se esté dando en términos generales una cierta reactivación

empresas con grandes dificultades y ahí siguen problemas y déficit estructurales

a los que no se les atiende y que evidentemente en caso de no ser atendidos van a ser origen de nuevas crisis y de nuevos

falta zaiola koherentzia falta zaiola ardatza falta zaiola norabide estrategikoa si estamos todos convencidos que la mayor preocupación de la ciudadanía es la economía y si hay por lo menos un consenso teórico sobre el hecho de que la industria es el eje vertebrador de la economía vasca

general pasar de puntillas y no hacer apenas mención

con errores de bulto y con manifestación de que claramente hay una falta de política estratégica el señor lehendakari en el pleno de política general nos dijo como uno de los logros de esta legislatura o de su gobierno que hemos adoptado la política ris tres como una novedad como decía mi aita noticias frescas se vende hielo

ris tres se adoptó hace ya tres o cuatro años y no se puede venir ahora a vendernos como una novedad

son ocho coma cuatro saltó una coma no solo en el discurso sino también en el texto

ocho que ochenta porque no hay otra política de compensación territorial que la

a ser reducida su cuantía económica este año o que se mencione como un éxito el acuerdo en torno a ess bilbao en el cual lo que se ha hecho es recortar la inversión pública y por cierto solicitamos la comparecencia de la señora consejera de educación para que nos explique cuáles son sus planes

tampoco se habló en el pleno de política general sobre el fondo que llevamos

de la política industrial del gobierno y en el pleno de política general el lehendakari no dice absolutamente nada sobre esto entonces es lógico que lleguemos a la conclusión

y que además no es fruto de la incompetencia ni de la maldad es fruto de una decisión

ideológica y económica neoliberal que lo que dice es la mejor política industrial es la que no existe y yo lo comenté en alguna comisión que cuando miré a ver quién había dicho esa frase que pensaba que había sido alguien de la escuela de chicago o milton friedman me di cuenta

de industria socialista pero bueno parece ser que tiene seguidores y que piensan

diseñar política industrial es a los empresarios y que el papel del gobierno

cuando este gobierno nos presenta sus quince objetivos estratégicos y ya hablamos

sobre la falta de ambición absoluta de esos objetivos de país

en qué situación estamos en el veinticuatro qué objetivo es ese estratégico de país qué ambición es esa

que se hagan planes quinquenales no estoy hablando aquí de cosas absolutamente extrañas pero me viene a la cabeza una frase

que decía elegimos ir a la luna no porque era fácil sino porque era difícil y así es como se lleva a un país a conseguir objetivos objetivos realistas pero complicados que supongan un reto como país y articulando las fuerzas productivas sociales y económicas de ese país para conseguir esos objetivos

per se y por pura inercia se va lograr dónde está la ambición dónde está el liderazgo dónde está la política dónde está la dificultad se ponen

general el gobierno ante la economía se conforma con ser notario de lo que está pasando

es altamente preocupante necesitamos proponernos objetivos

no solo para responder a las situaciones de crisis como las que estamos viviendo

hay que tener ya tomadas precauciones y medidas esas crisis inminente antes de que estallen porque luego a veces

no nos da tiempo y vamos demasiado tarde no solo se trata como decía

protocolos ágiles que no tengan que estar los trabajadores y trabajadoras

se ponga a disposición de las empresas para poner todos sus recursos a favor de la salvación

de financiación y mecanismos que se puedan activar de forma automática en estas situaciones y no tener que ir improvisando empresa por empresa eta gainera behar dugu

ardatzaz behar dugu ehun industrial teknologiko eta aurreratua y seguimos encontrándonos con unas empresas donde predomina el bajo valor tecnológico

que no sigamos anclados en ese ridículo en ese vergonzoso siete por ciento de energías renovables que se produce en este país y hacer también de esa transición energética una oportunidad para desarrollar tecnologías e industrias necesitamos corregir los desequilibrios territoriales cuando vemos que eskualdes enteros como la margen izquierda meatzaldea enkalterri oarsoaldea o aiaraldea que tuvieron un próspero

en la absoluta marginalidad y que las pocas iniciativas que se hacen son por petición de otros mientras el gobierno no dedica una intervención estratégica a la corrección de estos desequilibrios territoriales necesitamos

anclado en el país donde no se den más casos como gamesa itp euskaltel

necesitamos diversificación productiva más producto final

que no esté al dictado de los empresarios porque una cosa es defender las empresas y otra cosa es defender a los empresarios hay que prever las situaciones hay que actuar

pero falta modelo falta modelo y lo que hay en estos momentos es puro seguidismo hacia la patronal puro seguidismo hacia un confebask que diseña en este país la política laboral la política fiscal la política económica y la política industrial esta es la foto

esta es la foto de este gobierno cinco consejeros y el lehendakari reunidos en pleno con la patronal esto no es una reunión ordinaria

esto es un pacto de vasallaje esto es un símbolo de sumisión cayendo la que está cayendo en política laboral con todo el problema que tenemos con los sueldos con la fiscalidad con la política industrial esta foto que se toma en julio

empresas es una foto que dice vosotros decir por esa boquita que este gobierno va a cumplir y mientras tanto tenemos

que sustenta este gobierno el señor ortuzar haciendo unas declaraciones incendiarias

yo no he oído a ningún gobierno decir frontalmente a los sindicatos nos vais a tener enfrente mientras hay vasallaje hacia la patronal a los sindicatos se les dice que se les va a tener enfrente

una mediación para reconstruir las relaciones con los sindicatos que actualmente tiene prácticamente rotas pero desde luego

de forma tan descarada por la patronal no es un gobierno que tenga en cuenta los servicios de la mayoría espabilar que nos estamos jugando mucho

egun on denoi en primer lugar desde luego trasladar desde nuestro grupo parlamentario de nuestra coalición elkarrekin podemos

con las y los trabajadores miles en este momento que tienen en riesgo sus puestos de trabajo en diferentes

diferentes empresas industriales y que es precisamente el tema de debate que se trae hoy a la cámara nuestro

en el mes de julio entendía ya también que esta situación era lo suficientemente grave como para plantear y así lo hicimos público la necesidad de que el parlamento vasco tuviera un debate monográfico sobre esta cuestión finalmente ese planteamiento que nosotros hacíamos

no recabó los apoyos necesarios y no tuvimos ese debate

este debate tenemos diez minutos para manifestar nuestra opinión al respecto y vamos a intentar explicar por qué nos parece una cuestión no solo grave

que de lo que estamos hablando no es una cuestión coyuntural y por eso entendíamos que necesitaba un debate monográfico no es una cuestión coyuntural sino que es la evidencia de problemas serios estructurales

que consideramos seguramente todos los grupos de la cámara o así lo he escuchado yo en más de una ocasión que tiene que ser el sector de la economía de este país y al que por lo tanto hay que dedicarle una especial atención la situación de gravedad se ha evidenciado en los meses de verano en una serie

de empresas con problemas graves que se conocieron y se hicieron públicos pero con problemas que venían con anterioridad que no eran cuestiones puntuales

sino que eran problemas que ya existían y que estaban en nuestras empresas industriales en muchas de ellas algunas muy importantes como se ha visto por ejemplo en el caso de la naval pero además de el encadenamiento de empresas

y de la que dependen miles de puestos de trabajo durante los meses de verano tenemos un segundo elemento que desde luego a nuestro grupo nos hace cuestionarnos

sobre si el problema es coyuntural como defienden los grupos que sostienen al gobierno o es un problema estructural como defendemos desde nuestro grupo hay elementos indicadores que van mucho más allá de lo que hemos conocido este verano el peso de nuestra industria respecto al pib es

se ha hablado aquí sobre los objetivos explicados por el señor urkullu de subir del veintitrés y pico veinticuatro por ciento al veinticinco por ciento

antes de comenzar la crisis o de que la crisis impactase en nuestro país en euskadi los porcentajes estaban en el veinticinco por ciento cuando anteriormente este país había tenido un peso de la industria mucho mayor por lo tanto

y así lo entendemos nosotros para intentar comprender o admitir que el problema es estructural y no es ni un problema producto de la crisis que lógicamente ha incidido y nosotros desde luego no vamos a negar una realidad ni de que es un problema coyuntural de una serie de empresas

o simplemente por malas gestiones han entrado en crisis en este verano y un tercer elemento que nos hace a nosotros reflexionar

es coyuntural o estructural la opinión de los sindicatos ya sabemos que para algún grupo parlamentario o para algunos grupos parlamentarios quizás esto no sea relevante

en este caso de los sectores industriales y todos los sindicatos del país con las diferencias que sabemos que mantienen entre ellos en muchas cuestiones

en decir que no es una cuestión coyuntural todos han coincidido en decir que es una cuestión estructural y todos han coincidido en criticar la política

a la política industrial del gobierno vasco como del problema y no como parte de la solución en estos momentos por eso nosotros mantenemos esa posición creemos que es un problema estructural

del gobierno no porque haya habido una serie de empresas que han entrado en crisis grave este verano

es la consecuencia o la evidencia una de ellas precisamente de ese fracaso de la política industrial del gobierno vasco nosotros queríamos señalar hoy tres elementos

al menos tres elementos en el tiempo que tengo que creemos que han de ser corregidos y que creemos que evidencian también

es la falta de alternativa real y digna a los miles de puestos de trabajo que se pierden y que se han perdido durante años en el sector

como he dicho antes el que debía ser el motor de la economía porque no es solo crear puestos de trabajo que compensen los puestos de trabajo que se pierden

son puestos de trabajo que tenían unas condiciones más o menos dignas puestos de trabajo más o menos

y los nuevos puestos de trabajo que se crean por el cambio de peso entre los sectores de nuestra economía y por las nuevas normativas laborales que lo facilitan nos llevan a unos puestos de trabajo en condiciones mucho más precarias

de los contratos que se hacen son temporales etcétera etcétera ya hemos hablado de esto muchas veces un segundo elemento

la más que evidente falta de control por parte de la administración por parte del gobierno vasco del dinero público

a empresas y del dinero público que se destina a empresas en crisis esto se ha evidenciado también en varias de las empresas que han estado en crisis

pero ya pregunte en esta cámara por el caso de cel y se me dio una contestación

y de la que el gobierno apenas sabía nada el caso de xey

de la mano de los sindicatos cuando ya estaban en él eso quiere decir que ponemos el dinero público que a nosotros nos parece bien para ayudar a empresas en crisis pero no hacemos un seguimiento de qué se hace con ese dinero público y son múltiples las empresas que han demostrado

que hay que corregir un tercer elemento porque se me acaba el tiempo la falta de transparencia hay mucha propaganda en este gobierno

pero luego nos falta información de qué se hace o como decía de qué se hace con el dinero público este verano

yo le vi en el telediario afirmar que había treinta y seis empresas a las que se estaba haciendo un seguimiento concreto por su situación bien yo quise preguntar para hacer nuestra labor parlamentaria y porque es un tema que nos ocupa y nos preocupa a nuestro grupo parlamentario quise preguntar sobre esas empresas

que sabía que no siempre tienen las mejores respuestas pero nuestra sorpresa mayúscula y nuestra indignación es que a doce preguntas por escrito sobre esta cuestión se nos ha respondido con medio folio

para doce preguntas concretas nos parece del todo impresentable

de no dar respuesta es decir que la información no puede ser pública cuando se preguntan cosas como a cuántos trabajadores afecta

no son datos no son datos que afecten a las empresas son datos globales

que a no ser que no tienen carácter público a no ser que el departamento pues haya concedido algún tipo de ayudas o algún tipo de actuación

alguna actuación ha tenido el departamento y ninguna respuesta se nos ha dado ni una respuesta a las doce preguntas que hemos hecho

decir que la transacción que nosotros hemos firmado con el grupo proponente tiene algunos elementos de nuestra enmienda que nos parecen muy interesantes

porque los trabajadores y las trabajadoras que están defendiendo sus puestos de trabajo no están solo defendiendo sus puestos de trabajo en estos momentos están defendiendo precisamente

que todos los grupos parlamentarios hemos manifestado al menos públicamente que entendemos que tiene que ser el motor de la economía por lo tanto ellos sí están en la calle

y defendiendo lo que nosotras y nosotros teníamos que defender con más ahínco y una cuestión para terminar sobre el planteamiento ante los sindicatos porque han criticado al gobierno y el gobierno ha tenido más de una salida de tono sobre los sindicatos y les ha dicho y en concreto voy a decir le ha dicho al sindicato ela que no puede meterse en cuestiones políticas

poco sospechoso de venir aquí a defender los intereses particulares de ela

y yo vengo a aquí a decir lo contrario los sindicatos tienen tanta legitimidad como tenemos las organizaciones políticas de plantear cuestiones sociopolíticas

pero no se les puede decir que no intervengan y que no tengan opinión sociopolítica tenemos un problema

y las empresas en crisis que se han evidenciado este verano son una muestra de

muchas gracias señora presidenta estamos saliendo de la crisis económica entre otras cosas porque españa está saliendo de la crisis económica

en general los pedidos aumentan y por lo tanto hoy yo quiero dejar claro que no es un debate de política industrial es un debate

algunas de ellas con muchos años de problemas de antes y que

podemos hablar de la naval con más o menos dos mil personas afectadas de cel doscientos treinta

cna fagor doscientos veinte general electric

unos trescientos y todo esto ha surgido

como noticias nosotros no vamos a hablar de fracaso de política industrial

en anteriores crisis económicas y hemos ayudado a todos los gobiernos

se tomen medidas para mantener apoyar y que haya mejor

pero sí tenemos que reconocer que cada una de estas empresas es un problema evidentemente distinto cada una tendrá responsables o no de por qué han llegado a esa situación

labor del gobierno del gobierno vasco en esta materia y en esta situación y tenemos que decir que ha habido muchas declaraciones en los medios de comunicación desde el mes de julio agosto declaraciones contradictorias no vamos a entrar en el capital de ninguna empresa

estamos dispuestos a entrar en el capital de las empresas y todas estas declaraciones sorprendentes y contradictorias

se realizan en la prensa y lo que da a entender es que no hay una dirección no hay una dirección en esa política industrial o qué plantea el gobierno

que se plantean y la falta de rumbo es evidente cuando se está planteando que no vamos a entrar y a la semana siguiente estamos dispuestos a entrar pero luego no sé si me dejan o no me dejan todos sabemos que hay mecanismos que permiten en la unión europea

y luego me referiré a ello pero lo que no puede ser es que el gobierno esté en los medios diciendo sí y no

y sin explicar por qué segundo cuando empiezan a salir las noticias

a mediados de julio el gobierno se saca de la chistera el plan industrial

es que nosotros lo pactamos con los presupuestos claro es decir cuando aquí se aprobaron los presupuestos y vino la ley de presupuestos y nosotros negociamos con el gobierno los presupuestos

era que además del plan de ayuda a los emprendedores tenía que venir el plan

claro y nosotros tuvimos alguna reunión con la señora consejera para ese plan antes de todo esto antes de todo esto

no es una medida para paliar yo que sé la crisis de la naval evidentemente pero es lo que vendió el gobierno a mediados de julio

sí sí yo también leo la prensa yo también leo la prensa qué consiguió el gobierno con eso

grupos más mayoritarios de la oposición ya de entrada estuvieran en contra del plan industrial sin haberlo leído porque esto es otra de las características que tenemos en este país ya lo pusieron a parir

mal usando el plan industrial yo le voy a

le voy a dar un dato que es común a todos los miembros del gobierno en estos tres meses que han pasado y que estamos pasando con esta situación le voy a dar el dato el gobierno a este parlamento no ha venido a explicar nada

sino que sigue sin venir a explicar nada y ayer nos dijeron que a lo mejor en noviembre a mediados viene a explicarnos

qué se hace o qué se va a hacer cuando el propio lehendakari nosotros pedimos la comparecencia del gobierno el cinco de septiembre porque es que el día treinta de agosto el lehendakari dijo que había treinta y seis empresas afectadas

oiga nos parece muy grave nosotros conocíamos las que salen en la prensa

alguien debería explicar algo nadie viene a explicar nada ni cuando se les pide ni a petición propia

y esto sí es una política común de este gobierno durante estos meses con todas estas empresas con lo que está pasando también me sorprende yo creo que todos nos sorprendíamos cuando el lehendakari se hacía la pregunta de cómo es posible que una empresa con carga de trabajo

esté en quiebra o en suspensión de pagos hombre y yo creo que la señora consejera debería informar más

porque la señora consejera sabía como todos sabíamos hace mucho tiempo cuáles eran al parecer las circunstancias que estaban llevando a esa situación entonces claro es cuando menos sorprendente que el lehendakari el treinta de agosto diga

yo creo que la señora consejera durante un año al menos ha tenido tiempo y posibilidad de explicarle cómo era posible que ocurriera eso y aunque

cierta imaginación hace un año

más de un año ya pero hace un año el gobierno vasco

y nosotros se lo dijimos y se lo reconocimos a la señora consejera y le animamos a que lo pusiera en marcha que era el famoso fondo de inversión

ya sabemos que tiene problemas con bruselas pero sabemos que se pueden hacer y se pueden solucionar

que no sé si los socios del gobierno son capaces de ponerse de acuerdo porque claro si queremos que empresarios privados entren

algo tienen que recibir a cambio verdad y el caso es que a día de hoy se ha pasado más de un año

en comisiones antes del verano qué estaba pasando con esto

que si ese fondo hoy estuviera en funcionamiento a lo mejor sí o a lo mejor no

para hacer determinadas cosas en determinadas empresas no solo para atraer inversiones nuevas

estamos dispuestos a apoyar el plan de industrialización pero es evidente que ese fondo puede tener diferentes ramas para diferentes actuaciones

no hay nada y yo cada vez que pregunto en privado o en público pues estamos en ello

significa que se ha pasado un año y no tenemos nada y yo por lo tanto

están los representante de la naval allí arriba es evidente que nosotros no tenemos la solución

y el gobierno vasco es evidente que es su obligación y yo no tengo ninguna duda que la señora consejera

salgan adelante y vayan bien pero a la señora consejera y el resto del gobierno

porque también el señor consejero que se sienta al lado ha hecho declaraciones sobre la materia este verano hay que decirles una cosa su obligación es esa

a explicar las cosas las que se hacen las que no se hacen a lo mejor tienen respaldo o a lo mejor no tienen respaldo pero lo que es inadmisible es que con la que está cayendo

es posible que el gobierno comparezca a explicarnos algo de lo que está pasando con las empresas en crisis como la naval nada más y muchas gracias eskerrik asko

gracias presidente bienvenidos trabajadores de

que están en crisis que tienen problemas bienvenidos a este parlamento los socialistas vascos compartimos la preocupación por la situación que algunas empresas en crisis están atravesando hoy en euskadi porque tras la crisis nuestra economía nos ha situado en un escenario diferente

que durante estos años han sobrevivido a base de oxígeno de parches

un proyecto competitivo la situación de aproximadamente una docena de empresas en dificultades extremas ya era conocida las instituciones han estado trabajando con los propietarios y también de la mano

en algún caso la decisión empresarial ha sido desconocida también hay que decirlo por parte del gobierno vasco como ha sido el caso de edesa pero en el resto dadas las dificultades por las que venían atravesando se ha tenido posibilidad de ir analizando la situación y de ir poniendo remedios en el camino por tanto

en el mes de junio o en el mes de julio sino que

hacía unos meses antes y el departamento de desarrollo económico infraestructuras había venido trabajando con casi todas ellas con esas empresas que están hoy en día en crisis teniendo constancia de las dificultades que estaban atravesando esas empresas también es importante situar esas dificultades en el contexto

un contexto lo decía antes el representante de bildu que a través de datos macroeconómicos

el conjunto de los clúster que componen el observatorio de coyuntura confirman esa tendencia al alza esa mejoría

y ningún sector en concreto hace referencia a una situación de especial preocupación asociada a un sector en exclusiva la realidad de algunas empresas que se encuentran en situaciones muy difíciles muy complicadas y que están en crisis le sitúa en ese escenario de las dificultades que está atravesando

una salida satisfactoria y en ese ámbito de la mediación de la intervención también los socialistas vascos nos hemos prestado bien lo sabe el comité de empresa

estamos comprometidos pública y personalmente con ellos con esos comités que han solicitado nuestro apoyo y estamos trabajando con ellos y lo seguiremos haciendo en la medida que

porque sus aspiraciones también para el futuro de sus empresas son también nuestras aspiraciones también las de los socialistas vascos porque en política importan los trabajadores las trabajadoras pero importan también los empresarios los directivos y los propietarios de esas empresas y yo haría también un llamamiento aprovechando la coyuntura y el debate en el que nos encontramos haría también un llamamiento

analizar y reflexionar a los sindicatos a los representantes de los sindicatos para que se sumen también a esa apuesta por el diálogo social

en esta situación en esta coyuntura en euskadi y que algunos de ellos se niegan a formar parte de la mesa de diálogo social yo haría un llamamiento para que hubiese unidad sindical en ese aspecto del diálogo social que me parece clave e importante en estos momentos

en general se ha traducido en una disposición de instrumentos para empresas en dificultades instrumentos de mejora también competitiva

para generar empleo se ha traducido en actuaciones para la inversión en proyectos estratégicos y en una especial atención aquellas áreas que hemos catalogado

y en el caso de las empresas en dificultades el gobierno ha actuado con el criterio de ir atendiendo una a una cada empresa cada empresa es un mundo

sus problemas y sus dificultades y no tienen en algunos casos unas que ver con otras por lo tanto la resolución de los problemas debe de ser

y diferente a cada una de ellas en el caso que nos ha ocupado los socialistas vascos hemos presentado una enmienda junto con el grupo nacionalistas vascos

las acciones a desarrollar por el gobierno vasco nuestra enmienda dice así el parlamento vasco ante la grave y preocupante situación que atraviesan diferentes empresas vascas la naval cna xey cel ofita ingemar

manifiesta su apoyo a las personas trabajadoras afectadas así como a sus familias y se compromete a velar porque las instituciones públicas y los agentes socio económicos gestionen todos y cada uno de los casos desde la responsabilidad que atañe

a las instituciones cada una en el ámbito de sus competencias nos corresponde acompañar velar ayudar

y el mantenimiento de los puestos de trabajo este parlamento considera que la industria vasca en su conjunto las empresas en crisis

merecen el apoyo de esta institución y de toda la sociedad por todo ello mostramos nuestra preocupación y trasladamos nuestra solidaridad a las y los trabajadores afectados

dirigidos a salvaguardar sus puestos de trabajo y la actividad industrial

a que mientras se arbitran salidas se impulse las medidas pertinentes para que el impacto sobre la situación familiar personal y laboral de todas las personas afectadas sea el menor posible solicitamos a las administraciones y a todos los agentes implicados que trabajen de forma conjunta y activa para garantizar la actividad productiva y salvaguardar los puestos de trabajo sabedores de que la pérdida de empleo además de suponer un drama para la situación de las personas afectadas

a las zonas en las que se ubican las empresas en crisis instamos a las direcciones y propietarios de esas empresas a que realicen todos los esfuerzos necesarios

así mismo reclamamos que revaliden su compromiso con el desarrollo económico y social del país y con el empleo pedimos al gobierno vasco que en el ámbito de sus competencias utilice todos los instrumentos que puedan facilitar

el impacto de esta crisis sobre la situación de las y los trabajadores asesoramiento jurídico créditos etcétera en este sentido consideramos clave que realice el gobierno vasco cuantas gestiones de mediación e interpelación consideré oportunas con el fin de que las empresas inicien una auténtica negociación

que garantice la actividad productiva y el mantenimiento del empleo pedimos al departamento de desarrollo económico e infraestructuras que ante la amenaza de deslocalización

a modo de ayuda o subvención mantenga con las empresas

consideramos necesario que las empresas aborden con los trabajadores una negociación en términos racionales en la idea de buscar unas condiciones laborales dignas que al mismo tiempo permitan la estabilidad empresarial en unos momentos de dificultad así mismo

que mantengan informados en todo momento a los y las empleadas y a las instituciones de las novedades y avances que pudieran producirse reiteramos nuestro compromiso con el tejido industrial vasco motor de nuestra economía

que diariamente realizan nuestras empresas es fundamental a la hora de consolidar la reactivación económica del país esta es nuestra enmienda esta es nuestra aportación nuestro grano de arena en lo que pueda merecer la pena para que su situación mejore porque mejorará también

se aprobaba el plan de industrialización dos mil diecisiete dos mil veinte cuyo debate se señaló para este mismo mes de octubre parecía más lógico llevar el debate sobre política industrial a ese momento pero no

no un debate de cómo se construye sino destruirla a partir de desgraciados acontecimientos puntuales por mucho que se produzcan simultáneamente

y todo con el único objetivo de reprochar al gobierno vasco sin querer entrar a debatir en ningún momento la política que hay que desarrollar

que empezaba por solidarizar a esta cámara con los trabajadores afectados por las empresas en crisis continuaba instando a los diferentes agentes concernidos

en función de las tareas que tenían que hacer no les pareció oportuno aunque sospecho que estaban de acuerdo en la totalidad del documento pero preferían lucir un debate en julio de la diputación permanente de esta cámara como si hubieran cogido al gobierno en un renuncio sobreactuar y sobredimensionar

porque estaba empeñado en su debate monográfico a pesar de que se les insistió que ese debate monográfico estaba previsto y se va a realizar el dieciséis de octubre

eta erakundeei eskatuz indar gutxiarekin konponbideei heltzeko pero es verdad políticamente les pesa demasiado ir de la mano del pnv en una declaración sobre política industrial se lo voy a decir yo

somos apostadores decididos de la economía liberal de un modelo económico laminador de la clase trabajadora vasca y somos extractores del dinero público

pero es que son tan repetitivos que su discurso ya lo recitamos todos como un mantra a ver ese un discurso les serviría si lo escucháramos que les sale del corazón del alma

es un discurso oportunista político de buscarle el momento para explotar una situación coyuntural de unas pocas empresas para aprovecharlo

pretender provocar una sensación de malestar muy superior a la que realmente se está viviendo

estamos preocupados con lo que está ocurriendo y estamos trabajando bueno está trabajando fundamentalmente el gobierno vasco con intensidad para paliar y minimizar los daños pero en la medida que corresponde y no como si el país se estuviera hundiendo que no y mil veces no todo lo contrario por ejemplo

querían poner un altavoz no a lo que estaba ocurriendo sino a su crítica al gobierno señalando que el parlamento

a desarrollar una auténtica política industrial qué es lo que está haciendo

su la suya la de eh bildu auténtica política industrial pero claro el gobierno no hace entre otras cosas

ni ustedes lo saben y si me apuran ni existe si me atengo a antecedentes de su partido en las instituciones y su sensibilidad con hacer planes y programas

es decir que el gobierno no la tiene de tal manera que cada vez que una empresa sufre una crisis la que sea

ustedes le ponen ese altavoz que llevan todo el día en la mochila a la situación dibujan un panorama

eso sí el índice de producción de euskadi ha subido en un año

y el mes de agosto dato de hoy mismo el cinco coma uno por ciento según ustedes si durante cincuenta de las cincuenta y dos semanas del año no se produce ninguna crisis en ninguna empresa eso se debe a que las empresas lo hacen bien la coyuntura económica es favorable o los sindicatos mayoritarios son responsables pero el gobierno en su planificación parece que nada tienen que ver pero luego viene la verdad es que el gobierno tiene planes como el de industrialización que vamos a ver la semana que viene

esta misma semana y que gustó a los distintos grupos por cierto en los discursos gustó que lo debatimos es un plan estratégico de gastronomía qué es la estrategia de especialización inteligente el pcti la agenda digital la estrategia energética son planes planificaciones con el objetivo de avanzar a un sector industrial

en el que resulta enormemente difícil posicionarse desde la especialización

esos planes lo que tienen son soportes y palancas en los que las empresas se apoyan para crecer y así

que ese mismo mes del dos mil dieciséis zuk duela gutxi nirekin egon zara

herrialdeko metro karratuko es bastante frecuente que cuando las instituciones se acercan a sectores económicos escuchen quejas

me puede usted decir si escuchó algo de eso en alguna de las empresas a las que visitó que fueron bastantes por cierto soy testigo me puede decir si no escuchó algo distinto a un cierto optimismo muy autocontrolado

no exenta de temor escuchó alguna crítica al gobierno escuchó alguna crítica sobre falta de planificación eta bide batez

hain zuzen ere qué es el plan renove sino un aspecto puntual una de esas palancas de una planificación le puedo garantizar que si las cosas les fueran mal nos hubiéramos enterado en aquella feria

que sí incluso que han sido capaces de negociar con los trabajadores unas condiciones laborales que permitan mantener esa competitividad que también pero algo de la planificación

también tendrán algo que ver o para usted tampoco lo que no se puede concluir es que porque están en crisis naval xey fagor cna cel las que sean

como mucho podría usted decir que era una planificación incompleta que no era capaz de contemplar el universo de posibilidades que pudieran acontecer en el sistema económico industrial mundial y eso es cierto la planificación industrial del gobierno vasco no lo contempla todo

y sobre todo no contempla el modo de gestionar de todos y cada uno de los empresarios de las empresas vascas porque en definitiva cuántas empresas van a cerrar este año

cuántas van bien cuántas están ampliando contratos e incrementando plantilla mire según usted

según nuestro grupo las primeras son primero

un fracaso de una empresa y pudiera que una limitación de una planificación

y las segundas son un bien hacer de las empresas y un saber aprovechar las ventajas de una planificación del gobierno eskerrik asko eskerrik asko tellería jauna

cuál es la actitud de la patronal y estamos viendo cuál es la actitud del gobierno y la actitud del gobierno como ya dije en otro debate no es la de intentar ni siquiera mediar ya no digo que se ponga

porque yo no digo que el gobierno no tenga que tener relaciones con las organizaciones patronales por supuesto que tiene que tener

tan abierta en una foto que lo que está diciendo es estamos realmente con vosotros cuando esa foto no se la puede sacar con los sindicatos porque sus políticas hacen que los sindicatos no estén de acuerdo con el gobierno y es normal que los sindicatos ante una patronal que está imponiendo una política fiscal fíjese que en este parlamento

que está llegando a neutralizar las opiniones de una mayoría política del país y está imponiendo

del debate que tenemos ahí y de los problemas que está generando la acción de la patronal y en política laboral tenemos un acuerdo de este parlamento en el cual se pide una subida general de salarios y ya sabemos la contracampaña que se está desatando desde la patronal y sabemos el bloqueo que están imponiendo a la negociación colectiva y por tanto efectivamente no hay diálogo social pero no hay diálogo social

para imponer sus políticas y luego este gobierno le está bailando el agua y por tanto es lógico

muy consciente y muy activa por parte de la patronal para sabotear y para marcar la agenda política de este gobierno y que el gobierno está cediendo a esta presión y yo no sé si como decía el señor tellería esto es capitalismo extractivo pero yo le pediría no ya la literatura con la que usted ha vestido la historia sino el origen de los recursos con los que cuenta este gobierno quién está pagando impuestos en este país y cómo está evolucionando lo que se paga vía irpf lo que se paga vía iva y lo que se paga vía impuesto de sociedades y verá cómo los empresarios cada vez aportan una parte menor cada vez son más insolidarios

y si eso no es que los pobres sean los que pagan impuestos y los ricos

pues bueno llámelo como usted quiera y retomo el tema del fondo nosotros no vamos a aceptar un fondo de inversión industrial que sea un instrumento para dar beneficios fiscales a una élite económica eso no lo vamos a aceptar sí vamos a defender un fondo que sirva para anclar al país empresas estratégicas y para aportar en situaciones de dificultad financiación a empresas que lo necesiten

una declaración institucional hay tiempo para las declaraciones institucionales y hay tiempo para los debates políticos ustedes no pueden cercenar el derecho de los demás grupos a discrepar por mucho que crean que tengan razón yo también creo que tengo razón pero le escucho a usted y le doy la oportunidad a que contrastemos ese tipo de cuestiones

de discutir cuáles son las políticas más efectivas contra la violencia de género entenderemos que cada grupo podrá presentar sus propuestas y podrá haber discrepancias porque estos trabajadores y trabajadoras lo que necesitaban no es una declaración con la que pueden estar muy de acuerdo una declaración de buena voluntad por supuesto que sé que usted tiene buena voluntad y como decía

que las empresas sigan abiertas pero esta gente no necesita una palmadita en la espalda

de porqué se han dado bandazos de porqué han fallado los mecanismos predictivos los mecanismos de previsión y por qué luego han fallado una vez que han estallado las crisis los mecanismos para hacerle frente y eso se tiene que hacer a través de un debate político

política claro el problema de traer el discurso escrito es que no se escucha lo que se dice anteriormente

yo creo que he hecho aquí un análisis en el cual sin caer en el catastrofismo ni negar algunos de los datos macroeconómicos he hecho lo mismo que hacemos

que puede evolucionar en positivo pero vamos a la letra pequeña y ahí vemos que detrás se esconde precariedad o

no niego la mayor de los datos pero sí entiendo que hay problemas estructurales

amaitzen joan y desde la autocomplacencia desde luego no los vamos a resolver sino a través del debate el debate que por supuesto no termina hoy sino que terminará
en el debate del plan industrial donde usted podrá entender que efectivamente

afirmación o acusación de eso que ustedes a veces

como eslóganes fáciles en mi anterior intervención no he hablado

de liberalismo etcétera al contrario yo he argumentado

por qué razón nuestro grupo creía o cree cree y continúa creyendo que estamos ante un problema

en el principal sector de nuestra economía y en el que tiene que ser como he dicho antes el corazón de nuestra economía y no ante un problema coyuntural por lo tanto nosotros no aceptamos las acusaciones de pretender frivolizar con el tema ni querer sacar rédito político de una auténtica desgracia que es la de que un montón de empresas hayan entrado en una situación muy grave de crisis durante los últimos meses

y he dicho y eso comparto con varios de los grupos que han intervenido que la situación de crisis de estas empresas no ha venido de repente existía con anterioridad y eso lo ha reconocido también

creo que lo reconoce el gobierno y por lo tanto este es un elemento que a nosotros nos lleva a plantearnos que tenemos un problema

que estas cuestiones en empresas algunas de ellas que son estratégicas o que deberían ser consideradas estratégicas por sus diferentes elementos

si tienen problemas en el tiempo sostenidos en el tiempo que no somos capaces

de política industrial cuando

saltaron todas las alarmas ante la acumulación de casos de empresas en graves problemas de crisis el gobierno anunció un día que iba a presentar y así lo llamó

eso sí es salir a los medios de manera efectivista a decir bueno tenemos aquí esto

que se presentaba un plan de choque especial por todas las empresas que estaban entrando en crisis en ese momento y que el gobierno entendía que eran problemas coyunturales de esas empresas y lo que se presentó ese plan industrial que además como se ha dicho aquí ya venía siendo elaborado por lo tanto no estamos ante una cuestión coyuntural nosotros nos mantenemos en esa posición y desde luego no queríamos un debate monográfico

ni para aprovecharnos políticamente de una cuestión que nos parece gravísima y que yo desde luego jamás haría como trabajador que soy porque

son con lo que nosotros y nosotras podemos vivir y yo el día de mañana cuando salga de esta cámara tendré que volver a buscar un puesto de trabajo

jamás con estas cosas yo comparto cuando se hacen llamamientos al diálogo social y a la unidad sindical absolutamente pero en muchas de estas empresas no hay división sindical al contrario en muchas de estas empresas lo que vemos es unidad sindical

por lo tanto esta cuestión no tiene necesariamente que ver y porque como hemos oído en muchas de estas empresas la cuestión de los salarios etcétera no son la causa principal de sus problemas y por lo tanto

abordar estas cuestiones nosotros creemos y hemos argumentado yo he argumentado

hay esta errática o por qué falla esta política industrial nosotros como todo el mundo podemos estar acertados

que lo estamos o podemos estar equivocados pero lo hemos argumentado y no voy a repetir porque no tengo tiempo los argumentos pero hay algunos muy relevantes voy a incidir porque me quedan catorce segundos en la falta de control que hay

no puede ser que nos encontremos con empresas importantísimas que tienen participación pública importante y que el gobierno

de esos problemas seguiremos debatiendo y el dieciséis de octubre no va a haber un pleno monográfico sobre esta cuestión señor tellería

no es lo mismo y nosotros vamos a ser constructivos como efectivamente fuimos el otro día con el plan de emprendimiento y haremos nuestras aportaciones

sobre el alcance de estos problemas sobre si es un problema coyuntural que es su posición legítima o un problema estructural eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta es evidente que

no se puede evaluar porque una empresa vaya bien o mal o dos o tres o cuatro o cinco es una cosa

las cifras macro salen de las micros es la suma de todos ellos ahora yo lo que no entiendo en algunos

esto de venir a demonizar a los empresarios a confebask

o de empleo que quiero recordar que se trata de crear

o como ayer asistimos cuando comparecieron el comité de empresa de la naval hay que buscar cuanto antes un empresario para resolver los problemas de la naval

uno con perdón no lo entiende mucho como tampoco entiendo que se mezcle impuesto de sociedades con empresarios porque los empresarios como los trabajadores pagan su irpf el impuesto de sociedades lo paga la empresa y sale del dinero de la empresa es más el impuesto de sociedades se rebajaría en cualquier empresa sí se sube el irpf si se sube el sueldo de los trabajadores

porque claro claro porque habría menos dinero

lo que no termino de entender cómo a estas alturas del siglo veintiuno

estos discursos confundir a la empresa con el empresario

a muchas empresas intentando perjudicar al empresario sí y nosotros desde luego ahí evidentemente pues no podemos entrar y hombre no sé porque el señor tellería ha puesto

de la maquinaria porque yo creo que usted se sentaba allá por ahí en el año dos mil nueve cuando nosotros lo planteamos

que su partido le pareció fatal hizo varias iniciativas pidiendo que se quitara y no estaba en ningún plan industrial pero luego sí está

pidió que se siguiera poniendo en aquella legislatura luego bien

parece que al principio parecen mal y luego se demuestra que son buenas por qué

reinvertir parte de su dinero mejorar su maquinaria y mejorar su competitividad y es evidente que son medidas que hay que tomar y que hay que tener y que sí que habría que incluirlos y que están ya incluidos en los planes de industria del propio gobierno y

de dar trigo también en el congreso de los diputados no hace mucho oíamos hablar del trigo y de los tractores

si pasamos del sector primario y nos centramos en el de la industria todos y entre todos conseguimos ponernos de acuerdo

se pueden hacer más fáciles y mejor desde luego nosotros no estamos a favor de los sindicatos no estamos a favor de los empresarios pero nosotros les oímos a todos y nosotros tomamos nuestras decisiones no vamos a remolque de nadie pero también es evidente que para que las cosas funcionen

si hay un acuerdo de todos los sectores sociales incluidos empresarios y sindicatos pues será mucho más fácil crear las condiciones para que se cree y se mantengan empleos industriales que en este momento pueden estar en peligro yo lo que les animo a todos

dentro de diez días conseguimos ponernos de acuerdo

pero lo que tiene que sentar es unas bases para que podamos incrementar esos puestos de trabajo industriales y que podamos incrementar el porcentaje del pib si todos estamos de acuerdo

pues pongámonos todos y pongamos las medidas pero las medidas que de verdad sirven si vamos a venir a hacer demagogia barata de que el empresario es muy malo y entonces señores no creo que venga ninguno porque desde luego no se le anima con algunos discursos a que venga nadie y nosotros lo que planteamos es todo lo contrario

mire los socialistas vascos creemos que la competitividad y la sostenibilidad de las empresas está en manos de los agentes que las conforman

desde diferentes perspectivas desde la regulación desde la fiscalidad las políticas industriales etcétera y poner a disposición de las empresas un marco y unos instrumentos

libremente puedan apoyarse para desarrollar sus estrategias competitivas y yo hoy aquí he oído mucho discurso y poca política concreta he oído mucha demagogia y no he visto ni oído qué medidas se pueden plantear

medidas concretas para sacar a las industrias que están en crisis de esta situación

no de ley que presentaba bildu en la que mostraba su preocupación primer punto estaba contra la actitud del gobierno segundo punto tercer punto emplear todos los instrumentos que estén a su alcance

está en la enmienda que hemos planteado el grupo socialista y el grupo nacionalistas vascos mantener informados a los trabajadores

a las empresas de la crisis poner en marcha un protocolo especial está puesto también en el programa de gobierno cómo se va a actuar por parte del gobierno vasco con aquellas empresas

la de bildu y mostrar la disposición a colaborar con trabajadores y representantes en la gestión de las situaciones en crisis que es algo que se está haciendo por lo tanto

es la solución mágica a lo que los trabajadores y trabajadoras de las empresas en crisis están planteando ni nada que se le parezca eso sí mucho

y hoy en día en política en ninguno de los sectores que abarca la política es bueno tener una foto fija porque todo va evolucionando y hay que adaptarse

que van teniendo las diversas situaciones por tanto yo creo que

poner negro sobre blanco medidas que el gobierno pueda ir

para salvar la situación de esas empresas en crisis y en el acuerdo de gobierno que tenemos firmado entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista concretamente hay un apartado que se trata del apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la reestructuración de empresas

cómo se debe actuar y qué es lo que se viene siguiendo hay otro apartado de planes específicos de actuación en comarcas y municipios desfavorecidos que también tiene influencia en esas treinta y seis empresas que pueden encontrarse en situaciones con dificultades negro sobre blanco

hay un plan de industrialización que debatiremos próximamente para estos próximos años y esta legislatura y cuando se marca desde luego poca ambición por parte del gobierno yo tengo que señalar que no hace

que estábamos discutiendo en plena campaña electoral sobre cómo estaba

y en aquellos momentos y hago memoria porque algunos deben tener la memoria un poco frágil en aquellos momentos estábamos criticando

y eso para nosotros significaba una verdadera catástrofe era catastrófico aquel índice

bueno pues si eso no es por ambición por algún milagro será pero desde luego

y que tampoco me atengo a las religiones creo que es el esfuerzo y el trabajo el que está por detrás y desde luego los socialistas que asumimos también un compromiso de gobierno

hicimos una apuesta y estamos con ella creemos que se irá cumpliendo no sin dificultades seguro seguro nada es todo bonito y maravilloso pero en este caso yo sí haría

menos demagogia y más propuestas realistas nada más y muchas gracias

eskerrik asko mahaiburu andrea bien no he dicho que sea un pleno monográfico

es un monográfico sobre el plan de industrialización cuál es la política industrial del gobierno vasco cuál es la planificación industrial que ustedes ponen en duda

pueden aprovechar para colocar otra cosa es que ustedes se estén fijando solo ahora en las empresas en crisis vale pero estábamos hablando de planes industriales de planes industriales ahora

ustedes han criticado que no hay una política industrial la suya no tienen por qué tenerla no tienen por qué tenerla porque están en la oposición pero hombre

lo lógico es que presente la alternativa cuál es su alternativa yo todo lo que he oído todo lo que he oído es

o mediopensionista qué es más sólido

bien en cualquier caso el gobierno vasco

va bien que todos estamos de acuerdo en que las megacifras nos dan bien

el que está trabajando intensamente el problema es que hacer un protocolo unificado de todo no puede ser porque

cierro mi empresa en euskadi y me voy y al día siguiente veamos un periódico

parece que resuelve algo el problema ese tipo

el gobierno entra a engrasar no puede entrar a negociar el gobierno no tiene poder negociador en una crisis empresarial

entre sindicatos empresa y además la empresa es del empresario

el gobierno no tiene que estar ahí pero el gobierno ayuda asesora engrasa las relaciones y tiene planes

que eso es lo que se va buscando cuando tienen un plan de viabilidad entra y le financia con ese plan de viabilidad y si en un momento se puede

en el capital de la empresa minoritariamente siempre porque si no es así el otro día alguien dijo que a lo mejor se podía entrar y al día siguiente tenía tres motoristas de bruselas en la puerta de su despacho diciéndole que no se podía y estamos en europa para lo bueno y para lo malo entonces a partir de ahí

nosotros tenemos un planificación el gobierno tiene una planificación les puede gustar más o menos el día dieciséis la debatiremos por cierto desde aquí me ofrezco a que lo intentemos consensuar lo más posible lo intentemos pactar y tengamos el buen ambiente que tuvimos el en plan de emprendimiento me gustaría y desde aquí

me ofrezco a ello ahora les voy a es que después de lo que he oído

por ejemplo hace tres meses se terminaron las comparecencias de la ponencia de ezkerraldea meatzaldea oarsoaldea

antes de que lo redactemos el presidente de la ponencia tienen dos semanas

cero patatero por qué están esperando que alguien lo escriba y sacudir

saben cuántas aportaciones han hecho los sindicatos vascos cero

luego cuando este escrito en powerpoint lo criticarán pero cero de aportación

si alguien desde luego quiere ser alternativa de tener ofertas miren

no soy partidario de performance ni de fotos fijas pero mire

la consejera con el comité de empresa de la naval la consejera

la consejera cuatro consejeras con los empresarios y los sindicatos bien
esto es casanova jauna itxaron mesedez esto es los que han podido improvisar usted ha podido preparar pero yo no estaba preparado para estas performances y en cualquier caso

hablando de sindicatos podría añadir

dejara de tener fobia a los sindicatos mayoritarios menos mal que ha desaparecido en parte porque eso significaba para empezar que con los minoritarios podía tener fobia para empezar

un apartado para pedir a algún sindicato mayoritario

mesa de negociación que exista y se le ponga en pie que se siente en cualquiera que se le ponga y en segundo lugar hablando de fobias

porque por un lado así podrá pactar con más frecuencia y por otro lado y es por su bien por el bien de él

con la financiación del transporte público por qué bueno pues porque

en nuestras comunidades y lo es hasta el punto de que se está pidiendo desde muchos ámbitos que pase de ser un servicio público a ser considerado un derecho

a la movilidad de las personas un derecho a la movilidad de las personas independiente de sus condiciones personales y económicas que permita su desarrollo individual y social evidentemente cuanto mayor es el cumplimiento por parte de las instituciones de ese

cuanto mayor es su función social generalmente mayor es el coste del servicio y por lo tanto mayor es el déficit de explotación que tiene para que nos hagamos una idea

el transporte urbano de donosti el municipal apenas se autofinancia en una cincuenta y siete por ciento

y eso implica que necesita necesariamente el apoyo de las instituciones aquí en euskadi todas las instituciones apoyan o disponen de su propio transporte público

las líneas de ferrocarril el gobierno vasco ferrocarril tranvía y autobús diputaciones sus autobuses y los ayuntamientos autobuses microbuses servicios

prestamo de bicicletas sin embargo el problema que tiene la financiación

al ámbito municipal por un lado porque los ayuntamientos son

la financiación de sus competencias y por otro lado porque son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y por lo tanto las que tienen que dar respuesta inmediata a las demandas de esta ciudadanía para que nos hagamos una idea el autobús urbano de vitoria gasteiz le supone

bilbao supone treinta y dos millónes de euros a las arcas municipales el último año

baracaldo veinticinco millónes de euros en los próximos diez años y así indefinidamente

la financiación más difícil y sin embargo en euskadi

la financiación del transporte colectivo la ley municipal

exclusiva a los ayuntamientos vascos en materia

pero sin embargo no dice nada de la financiación se regula conforme al resto de la financiación de todas las demás competencias lo mismo sucede en españa no hay una ley

y únicamente a través de la legislación en materia de haciendas locales y de bases de régimen local

subvenciones desiguales subvenciones irregulares e imprevisibles que eso sí permiten que los municipios de más de cincuenta mil habitantes tengan unos ingresos de los que

los ayuntamientos vascos para que nos hagamos una idea valencia zaragoza reciben seis millónes de euros al año sevilla cinco y medio

granada dos coma dos y sin embargo los municipios vascos nada el único que ha accedido el año pasado a esta subvención fue el ayuntamiento de donostia y recibió

con estos mimbres con estos mimbres los ayuntamientos vascos tienen un problema de financiación de su transporte público municipal

los ayuntamientos que tengan problemas para financiarlo tienen dos vías una encarecer las tarifas dos no encarecerlas y por lo tanto dar un peor servicio si no tienen el dinero suficiente encarecer las tarifas

el suficiente nivel económico van a ver perjudicado su derecho su derecho

al desarrollo individual y social si los ayuntamientos asumen el coste de los bonos sociales

y es que las ayudas de emergencia social no cubren no cubren los desplazamientos de transporte solo por este concepto el año pasado dejó de ingresar dos coma dos millónes de euros adicionales por lo tanto tenemos un problema

que los municipios además de todo el resto de sus competencias ahora mismo tienen un problema para financiar las competencias del transporte

a día de hoy la aportación pública por viaje en vitoria gasteiz es de uno coma veintiuno euros en bilbao es de uno coma veintiséis están mucho mejor es solo medio euro por viaje pero aun así

los viajes de la ciudadanía qué posibles soluciones hay bueno aquí viene nuestra proposición no de ley evidentemente tener una ley vasca de financiación municipal

porque por un lado una ley de ese tipo nos permitiría garantizar ese derecho a la movilidad al que me he referido al principio

financiar el servicio público con unos criterios objetivos unos criterios objetivos que en nuestra proposición décimos que puedan ser el grado de cobertura del servicio la función social que se cubre y por lo tanto las tarifas sociales que se aplican

de los medios de transporte utilizados la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que tengo que recordar que el cuarenta por ciento del cambio climático lo genera el transporte la reducción de las emisiones contaminantes que también el setenta por ciento de las emisiones contaminantes se producen por parte de tráfico privado en las ciudades cualquier

y nuestra propuesta estaba abierta al consenso estaba abierta a las aportaciones de los grupos no se han hecho únicamente las he hecho los grupos que apoyan al equipo de gobierno

no era nuestra intención establecer los criterios que tuviera que tener una ley de este tipo cerrados tampoco era argumento

nos acogíamos a la posibilidad de que la ley de movilidad sostenible que está preparando el gobierno pudiera contener estos criterios y sin embargo tampoco eso ha sido posible

muy grave es un problema muy importante en la anterior campaña electoral en vitoria gasteiz hubo una auténtica revolución con el canon de la capitalidad

y tenemos que vitoria gasteiz está dedicando cincuenta millónes de euros en tres años a financiar el transporte público municipal sin tener ninguna ayuda

y por lo tanto me gustaría que los grupos valorasen en su justa medida la propuesta que hacíamos

hoy o no y evidentemente va a ser difícil que salga a delante el problema va a seguir mañana el problema va a seguir pasado el problema va a seguir en dos mil dieciocho y cada vez va a ser más grave porque los ayuntamientos cada vez tienen un problema de financiación más grave

siempre hemos concebido el transporte público en su globalidad no solo el transporte

como una apuesta de sostenibilidad y desde luego que en tanto en cuanto tenemos un transporte público entendemos que de alguna manera reconocido ese derecho subjetivo a la movilidad en tanto en cuanto no es un servicio excluyente o que requiera de algún requisito más allá del económico de pagar el billete para poder hacer uso del mismo siempre hemos concebido el transporte público no como gasto sino como

y por tanto pues bueno como un elemento de cohesión social también como un cómplice para el desarrollo económico en fin

es cierto que se tiene que realizar un gasto de apoyo vamos a decir añadiendo el transporte privado pero en definitiva creo que es

puedo compartir algunas cosas con usted pero primero considero que atendiendo al calendario legislativo el hecho de que el gobierno haya incorporado

una ley que es la ley de movilidad sostenible que en sus objetivos que en su cariz que en su definición coincide plenamente con

de gobierno cubre en buena medida gran parte de lo que usted

decir y es más me atrevería a decir que no solo parte de lo que usted dice sino que incluso considero que en sus objetivos es más ambiciosa incluso por qué porque usted

que se ha ceñido a la cuestión económica que está muy bien que yo entiendo que es algo que principalmente a las personas que hemos tenido responsabilidades de gobierno en una ayuntamiento pues es algo que generalmente nos genera cierto

ha repetido en más de una ocasión que los ayuntamientos no tienen ayuda económica por parte de otras instituciones para sufragar ese gasto y quizá

en este caso en euskadi por parte de las diputaciones forales que son los que realmente

cuestión competencia compartida con los ayuntamientos en el caso que usted apunta

que entre otras cosas sirve para financiar a los ayuntamientos y para que esos ayuntamientos presten servicios públicos a sus ciudadanos por tanto de alguna manera entiendo que ese flanco

el hecho también de que usted esté hablando única y exclusivamente del derecho subjetivo y únicamente estemos hablando del transporte

pues también me genera ciertas dudas en la medida en que de alguna manera si solo nos vamos a ceñir

que ese derecho que usted apunta no es un derecho universal

que cuentan con un transporte público propio y que incluso existen localidades

que no solo se va a cumplimentar a través o en los parámetros que usted nos apunta sino yendo más allá de todo eso como le decía

la ley de movilidad sostenible en nuestro programa electoral que como le he dicho antes está incorporada al programa de gobierno y decía que esta propuesta era más ambiciosa que la suya en la medida que va mucho más allá de la cuestión de la financiación que está muy bien que garanticemos una financiación para tener

competitivo eficaz y a un precio acorde a las necesidades a las circunstancias económicas no solo a nivel global sino a nivel particular de los diferentes colectivos a los que presta servicio pero entiendo que esa ley va más allá por eso le decía que entiendo que llegan ustedes

y un poco mal y un poco mal porque como le decía entiendo que le falta cierta sustancia a su propuesta

de movilidad sostenible tienen entre otros el potenciar el propio transporte público no vale con financiar sino que hay que potenciarlo hay que garantizar un buen servicio

en la cuestión del transporte urbano queda el flanco del transporte interurbano entiendo que bastante de lado

que la haga verdaderamente eficaz que no existan duplicidades y que por tanto no se genere un gasto añadido a las administraciones un gasto que puede ser innecesario que actualmente puede estarse dando que efectivamente esa ley contemple una cooperación económica y también tecnológica entre los propios operadores entre los distintos servicios que potencie intermodalidad y sobre todo también que ahí estoy de acuerdo con usted que impulse medios más sostenibles no solo haciéndolo más económico más competitivo sino que incluso que aporten al medioambiente

climático a mí sí me gustaría realizarle alguna pregunta porque yo

experiencia parlamentaria tanto en este parlamento como en las juntas cuando hacía bien una proposición foral o en este caso si me tocara hacer una proposición de ley o cuando menos avanzar en la necesidad de una ley creo que esas cuestiones de las necesidades deben de sustentarse con números con ejemplos no sé si de alguna manera ustedes han hecho el ejercicio de analizar qué coste

qué flancos deberían cubrirse para que verdaderamente la ley que ustedes proponen sea eficaz no sé si ustedes han valorado ese coste o verdaderamente

la ley que ustedes nos proponen por tanto yo

el voto contrario del grupo parlamentario socialista

momentos y habida cuenta de que el calendario legislativo está presentado ya contempla la redacción de ese anteproyecto de ley de movilidad sostenible

que el gobierno actúe que el gobierno trabaje y a la vista del anteproyecto presenten lo intentemos mejorar lo intentemos hacer más eficaz y más eficiente y sobre todo que consigamos que esa ley sea una herramienta útil
para mejorar ese servicio público tan importante como es el del transporte público gracias eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza

es decir entendemos que lo que se pretende con esta iniciativa era que el parlamento instara al gobierno a que elaborara y presentara una ley de financiación del transporte público municipal una ley sobre la financiación del transporte público

manifestaban en su exposición de motivos y por lo que ha manifestado hoy entendemos que eso era lo que se pedía principalmente nosotros creemos que tomando en consideración

nuestro ámbito municipal en los municipios vascos tenemos que tener en cuenta que

solo bilbao etxebarri y barakaldo disponen de un autobús de un transporte

y donosti y en araba gasteiz el resto de municipios no ejerce esa competencia propia siendo las líneas interurbanas

las que ofrecen el servicio de transporte público a sus vecinos esto es se plantea la necesidad de asegurar una financiación estable

los municipios quienes en el desarrollo de ese servicio propio de competencia propia deberían analizar el coste efectivo de los mismos tal y como ocurre con otros puede ser el alcantarillado la gestión de residuos

es verdad que la iniciativa que plantearon parece que guarda cierta relación con la parte

de la ley catalana de financiación del transporte público pero no podemos olvidar que dicha ley sí que tiene

creemos que dicho plan recoge entre los objetivos un marco de financiación coherente

y medioambientales que permitan desarrollar un sistema de transporte integrado que es lo que pedíamos

en los últimos años conscientes de la relevancia de disponer de un sistema de transporte integrado que fomente la intermodalidad

así como la interoperabilidad entre las tarjetas y sistemas que existen en los

entonces por todo esto que hemos expuesto y volviendo a remitirme al inicio de mi intervención nosotros vamos a votar en contra de su planteamiento

en la que lo que décimos es que creemos que es conveniente seguir desarrollando el plan vigente para articular en la futura ley de movilidad sostenible el modelo de financiación y los planes de viabilidad de transporte desde el punto de vista de su sostenibilidad

teniendo en cuenta todos esos aspectos que inciden en el mismo tanto económicos sociales o medioambientales

buenos días utilizo este turno para fijar la posición del grupo popular ante la iniciativa que nos ha presentado elkarrekin podemos

debería de contemplar la movilidad como un derecho subjetivo

acordes con la situación de las personas especialmente las más vulnerables y también nos dice que esa ley debe establecer un reparto de las aportaciones económicas a los municipios en función de criterios de rentabilidad social medioambiental del servicio

con usted que existe en muchos ayuntamientos problemas económicos para

los servicios que están obligados a prestar servicios para atender las necesidades de sus vecinos pero lo que no compartimos

cada servicio o por lo menos usted plantea este servicio por qué porque tenemos herramientas legislativas suficientes en este momento para algunos aspectos de lo que usted nos plantea y creemos que son herramientas que están sin desarrollar efectivamente porque yo creo que a estas alturas de legislatura todos sabemos los que estábamos en la anterior legislatura y los que se han incorporado

de euskadi por cierto que ninguno de los tres intervinientes ha hecho referencia a esta ley y me sorprende y me sorprende especialmente por los grupos que apoyan al gobierno

habla de la financiación de las entidades locales de los principios de actuación de las haciendas locales vascas del régimen de nuevas competencias y nuevos servicios municipales

muy claro la ley pretende una clasificación competencial que además de ofrecer seguridad jurídica

y de una financiación adecuada para asegurar la sostenibilidad financiera de las entidades locales de modo que permita garantizar una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía y además dice que es necesario la presencia de los municipios vascos en los órganos y en los procesos de toma de decisiones

sometidas a un grado de tutela no siempre respetuosa con las relevantes funciones que les corresponde y no siempre compatible con un auténtico respeto por la autonomía local que los municipios deben tener garantizada nosotros señorías creemos que el desarrollo de esta ley que por cierto

decía la propia ley que en un año tendría que tener un estudio

todavía no se ha presentado un estudio no voy a entrar más en esto porque mi compañero mañana lo planteará pero tenemos que tener muy claro por otra parte las competencias de cada administración gobierno vasco

de euskadi y coordinación con el resto de instituciones elaborará el plan en esa supuesta ley que dice que va a traer el plan de movilidad del país vasco pero es que luego tenemos las diputaciones forales desarrollar aquella parte del plan de movilidad que

podemos pensar en los territorios del país vasco y hacemos por ejemplo

el plan de transporte interurbano porque los municipios como ustedes saben son de tamaños muy pequeños no tienen desde luego planes urbanos para sus núcleos y por lo tanto es la diputación quien

para el territorio de movilidad por lo tanto también es muy importante que estos ayuntamientos tengan atención

y luego los municipios son competentes en la planificación de la política de movilidad urbana por lo tanto estos aspectos

en esa ley de movilidad sostenible anunciada para esta legislatura pero que ya hay un proyecto de la legislatura del señor lópez

grupo socialista de hacer la ley pero estamos en el dos mil diecisiete y aún

la elaboración de ese proyecto por lo tanto ya veremos cuando llega

proyecto de ley que desde el grupo popular entendemos debe contemplar medidas para garantizar las condiciones necesarias para que el sistema de transporte de la comunidad autónoma de euskadi sea accesible a todos los ciudadanos independientemente de que tengan o no limitaciones personales para desplazarse

de discapacidad de dificultades de orientación a las personas mayores pues que les ofrezcan nuevas y mejores opciones para poder desplazarse como un elemento

nosotros apostamos por potenciar el uso del transporte público que sea accesible para todos como decía igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía el señor becerra en su punto dos habla de derecho subjetivo a la movilidad nosotros nos

de garantizar la accesibilidad y que sea para toda la ciudadanía que sea asequible económicamente

a la realidad social que sea sostenible medioambientalmente económica y socialmente que sea de calidad

analice los impactos de la movilidad coste de oportunidad de impacto esto es muy importante y que también analicemos en las nuevas infraestructuras de transporte la viabilidad económica

el nuevo proyecto de ley nos pueda dar pero bueno es una incógnita no conocemos esto es lo que nos gustaría a nosotros que fuese

los grupos que apoyan al gobierno han presentado una enmienda una enmienda que les encanta sobre todo al grupo nacionalista vasco aquello de

que ya veremos cuándo empieza a desarrollarse pero vamos un plan que es de transporte pero es que estamos hablando aquí de financiación fundamentalmente fundamentalmente hablamos de financiación y luego de accesibilidad universal

o sea por lo tanto ustedes no hacen ninguna mención a la financiación ustedes realmente

la ley de instituciones locales tienen algún interés ni una sola mención

es la financiación de los municipios que lo dice tiene un capítulo específico

ninguna referencia ni en su intervención ni en la enmienda nosotros no vamos a votar a favor de esta enmienda

de dar una solución a la financiación de los ayuntamientos

señorías de verdad nos hablaba el señor becerra de lo que cuesta el transporte municipal en vitoria cincuenta millónes pero eso no ha significado

el transporte no haya atendido las necesidades de la ciudadanía y de esas personas más vulnerables porque yo he hecho una comparativa desde mayo del dos mil cogiendo el mes de mayo

a movilidad dos mil nueve dos mil diecisiete tres gobiernos municipales

nacionalista bueno las bonificaciones mensuales los bonificados mensualmente en el mes de mayo de dos mil nueve eran ciento sesenta y cuatro mil trescientos tres hoy dos mil diecisiete mayo de dos mil diecisiete son doscientos noventa y siete mil quiero decir

cuesta mucho al ayuntamiento de vitoria el transporte pero no se ha dejado de atender

de aquellas personas en situación más vulnerable por lo tanto no siempre está relacionado algo que ha dicho usted el coste el alto coste puede dejar a las personas en situación vulnerable desatendidas en este caso y hemos cogió al ayuntamiento que es al que más le cuesta el transporte por lo tanto

gratuitos mensuales también han subido quiero decir yo tengo aquí los datos

y podemos decir que aunque el transporte sale

las personas más vulnerables no están siendo desatendidas por lo tanto señorías nosotros

propio claro si usted es el alcalde de un municipio pequeño y se quiere plantear dar al vecindario una respuesta una solución

a ver si le financia o no y como eso es potestativo de que se suscriba un convenio pues va a quedar usted al albur de que la diputación

de ahí la necesidad de una ley de ahí la necesidad de una ley porque la ley es objetiva y la ley responde a criterios objetivos a criterios objetivos ahora que tenga que ser una ley específica o la ley de movilidad sostenible bueno eso es discutible yo estaba dispuesto a discutirlo con el gobierno y el gobierno no ha querido discutir el gobierno no ha querido discutirlo porque

ha dicho antes el señor tellería que los grupos de la oposición hasta que no está el powerpoint no hacemos propuestas bueno aquí vamos antes de que llegue el powerpoint porque cuando se hace el powerpoint ya no hay manera de arreglar la ley

ha dicho la señora lópez de ocariz que tenemos herramientas y ha mencionado la ley de instituciones locales la ley de instituciones locales va a depender

de cómo se haga la financiación municipal en general en europa el transporte público para evitar esos vaivenes y darle una estabilidad

específica con criterios objetivos francia alemania reino unido holanda cataluña también el problema que tenemos aquí en euskadi es el de la distribución competencial y también lo ha dicho la señora ugarte

andan a tortas a competencia desleal diría yo para ver quién le roba los viajeros de uno al otro de uno al otro porque ahora mismo

tienen una financiación pública que duplica la de los autobuses de vitoria y bilbao y cuadruplica la de los autobuses de donosti

ahora mismo pueden permitirse tener unas tarifas más baratas incluso mientras no haya una unificación tarifaria y llevarse los viajeros y lo puede hacer también el tranvía de vitoria el tranvía de vitoria tiene una triple financiación gobierno diputación y ayuntamiento el tranvía de vitoria cogió la línea más rentable de tuvisa y la convirtió en tranvía y estamos a favor del tranvía

pero tuvisa no tiene una aportación del gobierno no tiene una aportación del gobierno a día de hoy dependerá del convenio

el bus de donosti sí tiene un convenio con la diputación que le da seiscientos mil euros por los viajeros que

y eso a día de hoy es así eso a día de hoy es así es más el ayuntamiento de eibar que tiene un transporte público municipal

con quién lo tiene contratado con euskotren por lo tanto se transfiere los fondos municipales acaban

y seguimos teniendo un problema seguimos teniendo un problema que no se solucione aquí claro que no pero yo ahora mismo proponiendo unas soluciones o unas posibles vías de solución para garantizar el derecho de la ciudadanía el derecho de la ciudadanía a poder ejercer su movilidad libremente porque

son adecuadas coincido con la señora lópez de ocariz en que no necesariamente tiene porque verse perjudicada los bonos sociales y el acceso de la ciudadanía pero cuando los municipios tienen dificultades para financiarse para financiar el transporte público sino se perjudica

tiene que gastar cada vez más en bonos sociales pues igual no puede reponer los autobuses

con la que lo repondría si tuviera el dinero suficiente muchas gracias eskerrik asko becerra jauna

dinero es cuestión de dar servicio y muchas veces que la diputación sin necesidad de financiar a ningún municipio está dando un servicio entonces cuando se detecta una problemática de movilidad

a un ayuntamiento para que ese ayuntamiento dé el servicio puede ser la propia diputación directamente la que lo dé y me consta

ese flanco por eso en mi primera intervención le hablaba de la eficiencia del servicio no hablaba usted también de tarifas bueno luego le

nosotros o a nosotros no se nos podrá acusar de no potenciar tarifas cuando por ejemplo en gipuzkoa se están aplicando tarifas concretamente a determinados colectivos como pueden ser los jóvenes o los jubilados

que en ese sentido se está haciendo bastante se ha hablado del sistema de financiación de cataluña bueno parece que cataluña todo lo envuelve tampoco lo cogería yo como ejemplo

muchas veces puede resultar bastante tramposo en la medida que existe un montón de bonos yo conozco personas que para acogerse a diferentes tarifas llevan en el tarjetero

tienes que llenarla tienes un cupo fijo y si no lo gastas el dinero

ojo que hay sistemas que pueden parecer que son la panacea pero luego a la hora de la verdad si los analizas no son tanto y mire pues decía la señora lópez de ocariz cuándo llega

al calendario normativo tercer cuatrimestre del dos mil dieciocho bueno pues esperemos esperemos esperemos señora ugarte

soy de los que procura dar a dios lo que es de dios y al cesar lo que es del cesar

de colaboración interinstitucional entre su gobierno y el gobierno vasco entonces en manos del partido socialista y creo que fue un avance ojo y creo que la tarjeta mugi en muchos aspectos puede tomarse como ejemplo

en cuanto a gestión en cuanto a practicidad creo que supuso un antes y un después y de hecho creo que sirvió para que otras diputaciones lo pusieran en marcha y coincido con usted en que el gasto que puede generar nosotros no lo consideramos como un gasto sino como una

que cuando ustedes estaban en el gobierno que se incrementó vamos a llamar

millónes de euros hombre el dinero tampoco lo es todo y muchas veces se puede dar un servicio

normal había líneas de autobuses que hacían trescientos kilómetros a la semana para mover a una docena de viajeros pues normal que también se genere ese déficit quizá hubiera habido instrumentos mucho más sencillos mucho más eficaces y probablemente más económicos para llegar a esas localidades pequeñas que tenían un déficit en el transporte público

no soy yo mucho de iglesias pero doctores tiene la santa iglesia cada cual con su gestión lo hace como lo estima oportuno para mí en fin algunas líneas de autobuses que se podían haber resuelto de otra manera mediante otro modelo de transporte y de hecho hubo parte de concursos públicos para adjudicar líneas que fueron recurridos por tanto tan ejemplares señora ugarte tampoco

pero probablemente con ese déficit que usted generó igual daba para construir o para avanzar bastante en las obras del metro pero bueno

sostenible eficiente más rápido más eficaz que da a un servicio en este caso al metro de donostialdea

altísimo de población y que además es mucho más sostenible qué quiere que le diga para mí es una inversión

mucho la pena en fin en resumidas cuentas que espero y deseo que ese anteproyecto de ley satisfaga

sus demandas y si no pues lógicamente abierto estará el gobierno y abiertos estaremos los grupos que lo sustentamos para analizar aquellas propuestas aquellas enmiendas que presenten gracias

usted le reprochaba al señor tellería

es que no lo puede entender el powerpoint sería el texto legal en sí no el texto

el gobierno mande al parlamento un texto un proyecto

una iniciativa pero no no se trata no se trata precisamente

la señora lópez de ocariz que nos diga que es por pereza que hemos presentado esta enmienda usted que nos presentado ni siquiera una enmienda usted que lo sabe todo o que no le da pereza no presentar una enmienda cómo se puede comer eso es que no tiene ningún sentido

las podía haber reflejado en una enmienda sin ningún tipo de inconveniente beraz nik uste dut

concretar señor becerra nuestra idea es que tenemos herramientas suficientes

que habla de financiar y cómo financiar los servicios de los municipios da la oportunidad a los municipios están en determinados órganos donde efectivamente se habla de cómo financiar las instituciones y creemos que son unos foros importantes de toma de decisiones donde veremos el día

ya veremos si se resuelve porque aquí todo lo fiamos a futuro sí señor orbegozo yo no le voy a hacer los deberes al gobierno oiga

lo que tiene que hacer usted qué va a hacer a futuro hoy no tiene una el gobierno no ha presentado una enmienda con alguna idea a aplicar hoy

una ley de movilidad sostenible para cuándo hay orden de inicio de la ley no para cuándo

señor orbegozo le dice al señor becerra que le traiga el proyecto de ley redactado

qué tiene que hacer usted que no que están muy mal acostumbrados a que les hagamos todo las enmiendas para que luego ustedes las calcen

no ya vale pero que quieren vivir ustedes de las rentas de los demás pero que me está pidiendo

que es para lo que están ahí y así le impulsan también a su gobierno que esta lento que estamos en la política

y seguimos igual que yo no les voy a hacer más los deberes qué quieren que les traigamos enmiendas y entonces ustedes con eso hacen una suya propia

que no que ya vale eskerrik asko lópez de ocariz andrea

hacen referencia a que los sistemas e instituciones de educación superior para ser eficaces en el ámbito de la educación la investigación y la innovación deben estar conectados a sus sociedades

a la hora de enfrentarse a los retos sociales y democráticos de europa y lo recalco porque el sistema universitario

de la sociedad menciona también esta agenda porque la propia estrategia vasca universidad empresa

y específicamente este clúster responde a uno de los puntos de la agenda renovada para la educación superior la que habla de reforzar la colaboración entre la educación superior la investigación

las empresas y empleadores del sector público si yo recordaba que hace veinticinco años estaba haciendo cooperación educativa en una empresa por las mañanas

porque también las empresas públicas se han involucrado en la cooperación educativa

que han realizado estas cooperaciones en empresas públicas en ayuntamientos y en diputaciones la transferencia del conocimiento científico y tecnológico no debe olvidarse de los agentes

e instituciones y desde euskal herria bildu insistiremos en lo público

y si recordaba que hace veinticinco años estaba haciendo prácticas hace alguno más de veinticinco también voy a recordar que como representante

votábamos el cambio de horario para permitir facilitar a nosotros mismos en un futuro la realización de las prácticas educativas y esa la representación del alumnado

en falta en la composición que ustedes nos plantean en pleno siglo veintiuno el clúster de formación

no contempla que los propios interesados sean agentes activos desde luego

y además ese papel activo viene marcado también desde europa el espacio europeo de educación superior reclama una nueva figura para el estudiante como sujeto activo de su proceso de formación de hecho en el propio estatuto del estudiante universitario se establece que las universidades deben promover la participación

deben asumir el compromiso de corresponsabilidad en la toma de decisiones

pedimos que se incorpore una representación del alumnado vía los consejos de estudiantes beste eragile bat guretzat ere ezinbestekoa ere dena sindikatuena da

legebiltzarkideok desde elkarrekin podemos tenemos la máxima de que la diversidad enriquece por ello consideramos que es importante asegurar que los distintos consejos órganos equipos o como en este caso la composición de un clúster de formación universitarios esté formado por equipos plurales de personas

que de alguna manera representen las distintas visiones de los verdaderos protagonistas de las acciones que se ponen en marcha y les afecta directa o indirectamente es por ello que no tiene sentido no contar con la participación de los agentes sociales que son beneficiarios de las distintas acciones que se ponen en marcha en este caso dentro de la primero estrategia vasca de universidad empresa dos mil veinte

ciencia y tecnología de euskadi efectivamente carecía de la presencia de las y los verdaderos protagonistas del fortalecimiento del sistema universitario vasco

se contemplaba la presencia del departamento de educación del gobierno vasco la secretaría euskampus dos agentes grupo de pilotaje industria cuatro punto cero

la iniciativa de eh bildu proponía incluir en esta composición por un lado representantes de la economía social y los sindicatos y por otro agentes de representación del alumnado nuestra propuesta en base a la idea de conformar equipos de trabajo plurales que cuenten con la participación de las y los verdaderos protagonistas nos pareció lo adecuado

la presencia de ningún agente u organismo que vele

es por ello que una de las propuestas que hacíamos en las enmiendas a la totalidad que presentamos era la relativa a integrar la dirección de igualdad de la upv

en la composición de este clúster con el objetivo de velar por los principios generales de igualdad de oportunidades y no discriminación que deben regir y orientar todas las actuaciones de las instituciones vascas incorporar la perspectiva de género en todas las acciones de clúster para contribuir a eliminar las desigualdades y promover la igualdad de hombres contribuir a que los ámbitos de la ingeniería ciencia y tecnología de euskadi altamente masculinizados sean sectores cada vez más paritarios aprovechar también el potencial de toda la población porque esta sociedad cuenta con la generación de mujeres más y mejor cualificadas de la historia asimismo

un órgano paritario tal y como indicar la ley de igualdad los poderes públicos vascos deberán adoptar las medidas necesarias para el equilibrio en los distintos ámbitos

elkarrekin podemos apoya medidas que hacen alusión a la necesidad de poner en marcha normas correctoras de la desigualdad de género tanto en la elección de los grados universitarios

debido a que las mujeres son minoritarias en las áreas tecnológicas

en los datos de matriculación según el último informe elaborado por emakunde instituto de la mujer ingeniería y arquitectura siguen siendo un área

alumnos setenta y uno coma ocho por ciento en general las enseñanzas técnicas principalmente las distintas ingenierías se mantienen como áreas con un claro

en definitiva cuanto menos avanzado es un país en igualdad de género más profunda es la diferencia a favor de los hombres en carreras técnicas asimismo

se marca como reto y por tanto como realidad la segregación de género por ámbito de estudio y esto se ve reflejado en la incorporación de las mujeres al mercado laboral hemos llegado a un acuerdo de enmienda de transacción con eh bildu que recoge la inclusión de la perspectiva de género en el clúster y no se entiende señoras y señores que defendamos políticas para igualdad entre mujeres y hombres y que estas no sean efectivas y se

y para finalizar hoy día mundial del docente elkarrekin podemos quiere agradecer a todo el profesorado como verdadero agente del cambio que trabaja día a día por una escuela vasca de calidad e inclusiva

sí gracias presidenta yo primero quiero sumarme al saludo de la señora larrion y la señora macazaga al

significativo para ello bien hoy debatimos una propuesta no de ley presentada por euskal herria bildu relativa a la

ciencia y tecnología de euskadi recientemente constituida en julio

presidido por la consejera de educación con esta iniciativa

la formación universitaria en los tres ámbitos mencionados con el fin de que responda a las necesidades del tejido productivo y persigue dos objetivos principales y creo que es bueno

por un lado forjar relaciones estrechas y estables entre universidades agentes de investigación y empresas que aseguren la colaboración entre ellos y así generar y transferir

por otro lado desarrollar ofertas formativas tanto de grado como de postgrado

y formar profesionales que sepan manejarse en el mercado productivo y que responda a las necesidades de este es decir que los alumnos tengan una estrecha relación con la empresa

participan escuelas y facultades de ingeniería ciencia y tecnología afincadas en euskadi

en san sebastián la confederación empresarial vasca confebask

con esta formación se pretende también que sirva para potenciar la coordinación entre universidades de euskadi porque se considera que hay

y para promover la internacionalización y para todo ello es necesario conocer en profundidad las necesidades que demanda el tejido productivo y mejorar e impulsar la colaboración

que tenga una relación estrecha tanto con las empresas vascas como con las instituciones a mi grupo

es la necesaria para que se vayan dando los avances necesarios en la mejora de la coordinación entre las propias universidades y en la relación entre estas y las empresas vascas

como otros grupos han incluido en sus enmiendas como pueden ser los sindicatos o la dirección de igualdad pero es verdad que estos agentes tienen también actualmente sus propios órganos de representación en cada uno de los sectores

donde hacen su vida habitual consideramos que con la participación con la que se ha constituido este clúster es la necesaria y la adecuada

porque incluyen las universidades de estas modalidades tanto de ingeniería como de ciencia y tecnología

no pecar de exceso cuando por otra parte existen canales de participación ya establecidos en sus propios órganos donde tanto agentes sociales como representantes del alumnado

en la toma de decisiones nos parece interesante la iniciativa que el clúster impulsado por la estrategia universidad empresa toma las aulas de empresa aulas laboratorio dentro de la propia universidad o escuela que son financiadas por las propias empresas para promover sus actuaciones y actividades

y las universidades que por un lado fomenta la formación de los alumnos y les acerca el tejido productivo y por otro lado se fomenta la investigación y esto hace que desde luego sea un referente en educación y en formación por ello nosotros defendemos en la enmienda presentada con el pnv en recoge la estrategia universidad empresa dos mil veintidós que incluye la formación dual

y que de una forma rápida y sencilla estos alumnos estén directamente relacionados con las necesidades de las empresas y del tejido productivo

fundamental a los objetivos del marco estratégico de la unión europea para la cooperación en educación y formación la estrategia de crecimiento y empleo de la comisión yo no dudo de la buena intención con la que la señora larrion y la señora macazaga han presentado sus aportaciones

de voluntarismo y de un exceso de buena intención para algo que tal como está conformado se convierte en algo perfectamente eficaz para los objetivos que se persiguen

el concepto de clúster es una nueva manera de ver y de entender las economías nacionales

los poderes públicos y demás instituciones que se están esforzando por mejorar la competitividad

a la hora de fomentar la competitividad todo esto lo recoge mejor explicado lo que pudiera hacerlo yo

en su libro ser competitivo donde define el clúster como un grupo geográficamente denso de empresas e instituciones conexas pertenecientes a un campo concreto unidas por rasgos comunes y complementario entre sí en este contexto y como ya

del nuevo clúster de la formación universitaria en ingeniería ciencia y tecnología de euskadi

constituyó la primera gran agrupación de centros universitarios de euskadi y en este sentido perseguía dos objetivos principales con los que nuestro grupo está totalmente de acuerdo y a mí también

por un lado el objetivo de forjar alianzas estables entre las universidades y los agentes de investigación con las empresas que aseguren la colaboración y retroalimentación entre ellos para generar y transferir conocimiento así como para compartir información sobre las políticas de ciencia tecnología e innovación de euskadi

dar respuestas eficaces y formar profesionales con alta versatilidad y alta empleabilidad en cuanto a su composición participan en el clúster las escuelas y facultades de ingeniería ciencia y tecnología de euskadi la confederación empresarial vasca confebask

enmarcado dentro del plan vasco de ciencia tecnología e innovación gracias a esta amplia composición se quiere potenciar la coordinación entre los centros universitarios de euskadi para dar respuesta a las necesidades formativas e investigadoras que requieren estrategias que superan

así como también aumentar la inserción laboral de los universitarios y su seguimiento además de promover la internacionalización y la innovación de la formación universitaria de hecho

gracias a la cual por ejemplo se prevé la puesta en marcha de una aula empresa universidad en el

y también en el área de la investigación una estrategia esta

del sistema universitario vasco para atender a los objetivos de la estrategia de especialización inteligente

tecnología e innovación euskadi dos mil veinte sí que me gustaría hacer un pequeño paréntesis para recordar en que consiste

ris tres euskadi la estrategia ris tres euskadi que supone una estrategia de innovación y desarrollo regional impulsada desde europa con el objetivo de favorecer la concentración de recursos e inversiones

claras sinergias con las capacidades productivas existentes y potenciales de la región

en el ámbito de la formación dual universitaria así como la definición del marco vasco de colaboración universidad fp en grados universitarios o la colaboración entre empresas y universidades de forma

universitaria teniendo en cuenta por tanto todos estos matices vemos que se trata de un clúster con representación plural amplia y competentemente representado

cabe aclarar también que en cuanto a su composición no podemos olvidar que el consejo vasco de universidades es el órgano de coordinación del sistema universitario vasco y de consulta y asesoramiento también del gobierno vasco

del sistema universitario vasco y así al consejo le corresponde entre sus funciones

y en particular la de promover las relaciones de las universidades con las empresas para las funciones que tiene encomendadas el consejo tiene también la potestad de crear

específicas y en este sentido tenemos que decir que la estrategia universidad empresa se articula en base a dos niveles el estratégico y el operativo y es

por lo tanto en definitiva lo que venimos a decir es que el consejo vasco de universidades que ya está

la composición de estos órganos y consideramos que la misma es plural y representativa de los sectores de interés que persigue este clúster asimismo debemos de tener en cuenta que sindicatos y alumnado ya cuentas con sus propios órganos de participación y opinión

y además en cada universidad de forma individualizada o singular

así como la de otros agentes de la sociedad civil por todo ello es por lo que creemos que no tiene sentido tratar de imponer esta dinámica que

continúe impulsando la estrategia universidad empresa dos mil veintidós promoviendo la colaboración entre facultades y universidades

nosotros a este punto tampoco hemos presentado enmienda

uno presenta una enmienda a algo que cree que puede mejorar

darle un mejor sentido y nosotros a esta proposición

encontrar sentido y voy a decir por qué yo creo que la palabra clúster se interpreta

en distintos sitios nosotros como la interpretamos y que creo que es la forma más extendida de ser interpretada

una cohesión de complicidad para llegar al mismo punto entonces cuando se nos proponía la inclusión

de tantos órganos y tantas instituciones etcétera etcétera nos parecía que no

sobre todo cuando un foro de este tipo su misión

proponer no tiene una capacidad de decisión total la capacidad de decisión total está en sus distintos componentes

esas instituciones que se pedía que estuvieran en el clúster esa es la razón por la que no hemos hecho enmienda porque nos costaba engarzar

incluso nuestra idea de lo que es un clúster y tal y como está

los objetivos no lo encontrábamos suficiente razón de ser para proponer

estos añadidos además también quiero decir una cosa que creo que es un peligro hoy en día

querer convertir en una asamblea cualquier iniciativa si hacemos eso vamos a perder gran eficacia

que tienen que liderar y que protagonizar determinadas iniciativas

en meros animadores socio culturales como si estuviéramos no sé en un hotel que el animador socio cultural anima a todo el mundo no sé qué no cada palo tiene que aguantar su vela para bien

ser representativo decidir y luego enfrentarse a la rendición de cuentas esto de amontonar todo tipo

de actores para que aquello acabe siendo como una asamblea a mí personalmente me parece

más que enriquecer la decisión que es un objetivo

lo que hace es paralizar la acción paralizar la acción y sobre todo en el caso concreto del clúster

que las decisiones se van a tomar en los distintos órganos que lo constituyen donde están representados las entidades que

sí que encontramos adecuado el añadido que ha hecho elkarrekin podemos sobre la paridad creo que compartimos

distintas maneras de verlo pero sí el impulso sí el impulso

la paridad obligada es muy difícil y hoy en día es cierto que en las carreras de ciencia y de tecnología hay mucha menor presencia de mujeres pero créanme

el otro día estábamos reunidos con representantes de la escuela pública

y ellos mismos nos decían que eso es algo que hay que empezar a inculcarlo en la primaria para cuando las personas llegan a eso y tienen que decidir qué asignatura tomar

es en lo que más estamos de acuerdo con la propuesta consensuada que se nos ha traído y qué vamos a hacer pues vamos a votar a favor de la enmienda que presentan los grupos que apoyan al gobierno y lo vamos a hacer

manzanas llevo peras traigo es una declaración no es una enmienda a la totalidad es una declaración una declaración con la que es no estar de acuerdo y eso nos lleva a botarla a favor pero sí que queremos decir que si queremos dignificar

juega en la discusión política las enmiendas los planteamientos etcétera

pero bueno cada uno que decida lo que quiera es nuestra postura y es una de las razones por las que ni a este punto ni en el punto anterior

no hemos hecho enmienda porque tendríamos que haber entrado al fondo y nos parecía que el fondo estaba equivocado para cerrar

que como iniciativa nos parece adecuada tendremos que juzgar por sus resultados pero nosotros echamos de menos algo y algo que verán ustedes como dará vuelta el viento y se volverá a poner en valor

y no hablamos de ninguna especialidad en humanidades y me dirán

por ejemplo arqueología hay empresas que se dedican a prospecciones arqueológicas en el país vasco por ejemplo

psicología creo que debemos lanzar una mirada entiendo que lo que más va a generar probablemente empleo que ahora es

que ha priorizado pero yo personalmente echo de menos una presencia aunque sea humilde de las humanidades porque sí hay empresas que se ocupan

de estudios de humanidades porque recuerden la ciencia

nos da conocimientos y nos da herramientas para movernos en la vida pero las humanidades nos dan sabiduría entonces rogamos a la consejera que en desarrollos posteriores incorpore este tipo de estudios en la estrategia vasca

a favor de la declaración que no enmienda de los grupos que apoyan al gobierno muchas gracias

yo creo que primero tenemos que tener claro cuáles son los objetivos que nos marcamos a la hora de crear el clúster y creo que los hemos mencionado varios de los

por un lado forjar alianzas estables entre universidades y agentes de investigación con empresas y por el otro desarrollar ofertas formativas de grado y postgrado y de formación

una asociación empresarial para negociar con los sindicatos para ser el interlocutor válido con la administración en un campo concreto para eso no hay que crear un clúster el clúster tiene que estar

que no pueden hacer de manera individual además pueden y en mi opinión deben incluir a las facultades universidades y otros fundaciones parques tecnológicos y científicos como además se da el caso de este clúster

creado cumple con una representación amplia y variada de la misma

bueno unos minutos no creo que vaya a utilizar todo mi tiempo

que si en el curso de los trabajos del clúster ven que es necesario que se incorpore alguien más por favor que tengan una mentalidad abierta y respecto de la intervención de la señora larrion lo que voy a decir es que yo tampoco voy a perder el tiempo hablando de lo que ha dicho

pero saben por qué no voy a perder el tiempo porque la señora larrion hay veces que

como miembros de su grupo tienen un discurso de odio hacia nuestro grupo y entonces como lo único que nos queda es la dignidad pues sencillamente no lo voy a comentar cómo dice cómo les reprocha ustedes una vez más de la mano del partido popular

y que lo que queremos es con ustedes ayudarles a conseguir que los ciudadanos vascos lleguen al mejor puerto posible y esos que hablan de tanta inclusividad etcétera etcétera es inclusividad de los que son mis amigos

los excluyo entonces denuncio desde aquí lo denuncio

expresiones que se podrían asimilar a expresiones de odio

es que nos importe porque con lo que hemos pasado podemos aguantar esto

pero me parece que es muy triste que en la sede de discusión y de debate de encuentro de todos los ciudadanos vascos

ya le digo no es una queja porque podemos aguantar esto y mucho más pero le aseguro que nuestra mano está tendida con la mejor de las intenciones para conseguir la mejor vida y el mejor bienestar para los ciudadanos vascos

gracias presidenta buenos días a todos y a todas

proposición no de ley sencilla sencilla porque lo que pretende esta iniciativa es poner en valor

que son las vacunas pero una vez más yo creo que se puede hablar de ella en un contexto donde algunos buscan determinados papeles de descredito o

de las vacunas y en algún caso quizá en nuestro entorno más inmediato no sea tan grave pero en algunos de los próximos

está haciendo mella de una manera lamentable de una manera negativa y desde luego si podemos realizar también aquí como se hace con las vacunas
isiltasuna mesedez una labor preventiva y seguir hablando de las vacunas como el gran

en el mundo bienvenido sea y esa es nuestra pretensión

de vacunación y de su puesta en valor permanentemente y ante los ataques que sectores antivacunas han traído en los últimos tiempos y han puesto de manifiesto los últimos tiempos quizá nuestro entorno

aunque expresiones de falaces críticas con las vacunas se ven últimamente pero cada día en muchos países incluso cercanos como

sobre falsos conceptos y falsas reacciones adversas de la inmunización por vacuna se ha llegado a decir incluso recientemente que determinadas vacunas provocaban autismo

ha vuelto otra vez a decir cuando ya estaba perfectamente desacreditada y descalificada científicamente una

su moda en algunas sociedades fundamentalmente estados unidos

que adquirió un cierto protagonismo pero que luego tuvo que pagar por sus falacias distintas asociaciones además de pediatría

de las medidas de inmunización de la población especialmente de la infantil y han denunciado distintas ofensivas eso lo han hecho

con sus efectos han dicho esos colectivos médicos y sanitarios

y enfermedades no solo infantiles y que además su seguridad

ya científicamente y lo sigue siendo cada vez que se da un paso en relación con la implementación de políticas de vacunación de estas características o sea que

confunde a la población y pone en peligro fundamentalmente la salud infantil también la de la población adulta por supuesto en relación con otro tipo de vacunas que tienen protagonismo también y ahora estamos en la antesala de la

poner en valor esta cuestión y advertir de los riesgo de quienes tratan de criticarla incluso desde el propio ámbito

recientemente además hemos podido comprobar cómo se han hecho públicas declaraciones o afirmaciones

y ámbitos masivos de opinión porque son algún medio de comunicación que de una manera falsa desacreditan las vacunas atribuyéndoles perjuicios o daños a la salud que en absoluto son ciertos y que se fundamentan en supuestas investigaciones vuelvo a decir como decía

y salud de la organización mundial de la salud o sea que es necesario seguir poniendo en valor las medidas que son destinadas a generar

estimulando la producción de anticuerpos y es necesario seguir estimulando la investigación y producción de nuevas vacunas que actúen sobre enfermedades que aún no disponen

sobre esa cuestión en sus calendarios en sus programas de prevención en sus programas de salud pública en sus programas de vacunaciones y lo hagan siempre pues de la mano desde luego de los comités y comités asesores de los comités científicos y de la sociedad científica

que en relación con estas cuestiones hemos querido traer una

una enmienda de transacción con los grupos que apoyan al gobierno también hemos tratado de recoger también ideas que hemos visto reflejadas en algunas de las enmiendas presentadas y bien ahí está decir son tres puntos el primero de ello s donde el parlamento vasco de conformidad con la

es bueno reconocerlo porque estas cuestiones no se les ocurre a los gobiernos de turno

grandes líneas de salud pública para todo el mundo la organización mundial de la salud y los principales organismo internacionales en materia de salud

es muy importante reconocer esto estamos en el decenio dos mil diez dos mil veinte es el decenio de la vacunaciones además en dentro de la organización mundial de la salud o sea que estamos en un marco de actuación

también décimos que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que a la hora de adoptar decisiones en relación con el calendario de vacunación la gestión de las campañas informativas sobre vacunas campañas informativas que son esenciales teniendo en cuenta nuestra realidad social se prioricen

teniendo en cuenta las recomendaciones del consejo asesor de vacunaciones de euskadi contando con su colaboración

en la toma de decisiones bueno son planteamientos que formulaba la señora blanco en su enmienda de totalidad que

asesor de vacunaciones un organismo al que conocemos al que hemos prestado también en este parlamento

al unísono con osakidetza al unísono con el departamento de salud al unísono con las sociedades

científicas al unísono con las sociedades médicas de pediatría o sea yo creo que es un elemento fundamental

instamos al gobierno vasco a que siga realizando y no solamente realizando a que siga a que refuerce en su caso en el caso de necesidad

campañas informativas sobre el calendario vacunal sobre las principales novedades en ese ámbito y sobre la importancia y conveniencia de la vacunación de la población yo creo que sí es el momento de reforzar campañas de información desde osakidetza fundamentalmente desde las instituciones públicas por qué

y que desde luego esta iniciativa instará al gobierno y el gobierno

precisamente por ese riesgo de descrédito de las vacunas que se está extendiendo más que en otros pero en francia y en italia eso está ocurriendo en estados unidos no digamos

que vacunar a sus hijos como hemos visto recientemente ayer mismo antes de ayer o sea que en ese sentido yo creo que hay que

con esa situación y por eso mismo las campañas públicas de reafirmar lo que es bueno yo creo que no pueden faltar y se tienen que reforzar por otro lado qué pasa en el país vasco que hay una deficiente

vacunación en relación con la gripe por ejemplo de los profesionales sanitarios que son quienes están llamados a vacunarse fíjese ustedes hacíamos una pregunta hace poco al gobierno vasco en relación con la vacunación del personal sanitario del servicio vasco de salud de osakidetza es decir en la campaña dos mil dieciséis se vacunaron

lo que es una cobertura del treinta por ciento de los profesionales

atender consultar tocar estar

las personas mayores es decir es posible que haya médicos que estén diciéndole

que tienen en frente se tendrá que vacunar y él no lo haya hecho y puede ser además uno de los causantes de una

también entendemos que en eso que solicitábamos en el tercer punto al gobierno vasco que refuerce campañas aquí hay un elemento también de seguir avanzando porque

esto no cambia es decir es imperceptible

es el treinta por ciento y eso hay que arreglarlo eso no puede ser

este tema se lo tome desde luego con seriedad porque yo he hablado con los médicos que llevan estas cuestiones

por esta situación que desde luego llama la atención sin más son planteamientos

las enmiendas son interesantes es decir el señor uria también

una serie de cuestiones que vinculaba a la práctica profesional a la ética profesional a los códigos de buen gobierno a la vinculación de los profesionales con las farmacéuticas algo que yo creo que tiene

y una entidad por sí misma ese debate es un debate paralelo o coincidente en algunas cuestiones y que yo desde luego

lo que quería llamar esta iniciativa más la atención es sobre las necesidades

prácticamente en la campaña de vacunación de la gripe de este año

dos mil diecisiete entendemos también esos riesgos que percibimos que nuestro entorno quizá ya hemos visto

pero que desde luego las campañas y las políticas de vacunación tenemos que recordar están siendo reforzadas en toda europa países como portugal como alemania como italia como francia están regulando están haciendo una normativa sobre ámbitos de obligatoriedad de vacunas estamos en españa y fundamentalmente

se está mejor se está bien pero corremos ese riesgo ya hemos visto que si corremos el riesgo

consideración anti vacunas tenemos un riesgo porque los profesionales solo se vacunan el treinta por ciento o sea

yo creo que estamos hablando de un tema muy importante alguien decía

es lo que quiere decir que la salud pública es la ley suprema y desde luego las vacunas son

consejeros lehendakari compañeros y compañeras

el parlamentario carmelo barrio del partido popular nos propone una proposición no de ley acerca de la bondad de las vacunas y propone que el gobierno se posicione sobre el tema y refuerce su posición informativa nuestro grupo parlamentario elkarrekin podemos

inconveniente el manifestar públicamente nuestro apoyo a las vacunas como principal método de prevención primaria del que dispone la salud pública en estos momentos

grupos pro vacunas seguras que se han desarrollado en distintos países de nuestro entorno no tanto en euskadi ni en el marco del estado español

con el autismo en mil novecientos noventa y ocho en el reino unido

y no fue relevante ninguna relación entre ambos situaciones de vacunación de la triple vírica y del autismo

expresó se retractó de la afirmación que había hecho

y fue un icono del movimiento anti vacunas dicho esto queremos manifestar nuestra extrañeza por la propuesta es como solicitar al gobierno que ir a la escuela es bueno o que cuidar la naturaleza o que ir a votar también es bueno en fin son asuntos de sentido común no tenemos nada que decir al parlamentario carmelo barrio sin embargo hay algunos problemas que subyacen a la propuesta que nos preocupan que queremos manifestar y que si están en los medios de comunicación de nuestro país

en nuestro territorio el primer asunto que quiero plantear es que la industria de vacunas

es un conjunto de multinacionales del mercado financiero más potente del mundo moviendo en estos momentos un capital mayor que la misma industria de armas de trata de blancas o de telecomunicaciones solamente en estados unidos en dos mil dos gastaron en vacunas bajo receta

verdaderos oligopolios en el sector que dedican del total de sus presupuestos el treinta por ciento

este es un problema segundo las compañías farmacéuticas compran políticos el último dato que he sacado de la época de bush y de los candidatos republicanos recibieron

también recibió clinton también recibió obama no tengo datos si recibió

los buscaremos compran medios de comunicación creando en múltiples ocasiones demandas inducidas en nuestra población

es muy complicado es por antropología es pura cultura es habilidad de comunicación compran a profesionales sanitarios pago continuo de congresos comidas hoteles de cinco estrellas etcétera

compran catedráticos compran funcionarios de organismos internacionales el último un funcionario de la organización mundial de la salud que fue miembro del comité

de la última no de la anterior epidemia de gripe aviar compran a funcionarios nacionales

este es otro problema otro problema solamente el diez por ciento del total de los presupuestos dedicados

de la población mundial precisamente a la que de los países empobrecidos donde recuerdo mueren según médicos sin fronteras casi dos millónes de niños y niñas menores de un año por enfermedades prevenibles por vacunas

ha denunciado reiteradamente esta escandalosa situación se investiga para productos

nuestras clases medias podemos comprar las vacunas o disponen de sistemas sanitarios que las ofrecen gratuitamente

están aún esperando la vacuna adecuada la vacuna eficaz y segura para prevenir los cientos de miles de muertes que ocasiona cada día cada año estas enfermedades los precios de acceso a las vacunas disponibles son demasiado caros para estas poblaciones

o la alianza internacional para la vacunación formada por la oms

y por la federación internacional de la cruz roja hacen año tras año un esfuerzo un gran esfuerzo

centenares de miles de niños y niñas por sarampión o cólera

la última remesa de dosis que han liberado estas alianzas para los refugiados

más de uno millón de personas expulsadas de birmania por limpieza étnica que están en bangladesh han confirmado que el veintisiete de septiembre les llegan novecientos mil dosis de vacuna contra el cólera veremos cuánta gente muere

señalar y por lo que nos vamos a abstener es que necesitamos una relación más ética con las compañías farmacéuticas las personas

los técnicos y los políticos que toman decisiones sobre la utilización de las vacunas deben someterse a un código ético como tienen los cargos de nuestro gobierno un código ético

los congresos se pagan a profesionales algunos de ellos intervienen en comités de expertos también en euskadi

en el calendario vacunacional de la vacuna contra la varicela o el intento de introducir en el mercado la vacuna

fue el cese fulminante de francisco salmerón garcía alto funcionario del ministerio de sanidad y consumo que fue jefe de la división de productos biológicos y de biotecnología de la agencia española del medicamento

por su oposición a la vacunación temprana de la varicela y su extrañeza por el coste efectividad a la consideración de la nueva entrada en el calendario de vacunas el preparado en concreto de novartis como vacuna para la meningitis b

alfonso alonso que nos lo podía contar mejor que yo porque yo tengo datos

recién me han mandado del ministerio pero le cesó nuestro parlamentario alfonso alonso francisco salmerón en la última carta que escribió de despedida a la ministra actual de sanidad

observaba lo siguiente y con esto acabo la observación de la cada vez mayor influencia de las unidades de márquetin

y la dificultad de distinguir el papel real de algunas sociedades denominadas científicas

ocasiones parecen claramente infiltradas

y transmutadas en órganos de adoctrinamiento y presión al servicio de las compañías farmacéuticas

en la sociedad española y uno de los técnicos mejor preparados nosotros nos vamos a abstener en la propuesta del parlamentario carmelo barrio es una propuesta es un buenismo estamos de acuerdo cómo vamos a estar en desacuerdo no compartimos las filosofías de las dudas pero quien hable de vacunas hoy

la compra venta de funcionarios y la situación que se está desarrollando creando situaciones altamente graves bajo el punto de vista ético en nuestra comunidad yo creo que es un trabajo

para hablar únicamente de la importancia en las políticas de salud pública de las vacunas como el elemento central de prevención primaria que sin duda apoyamos
y afirmamos gracias eskerrik asko uria jauna

señorías está muy bien que este parlamento hoy se posicione de la manera que lo va a hacer entorno a las vacunas y las campañas de sensibilización de las mismas

que hay otras muchas cuestiones que también habría que abordar tarde o temprano sinceramente tampoco creemos que sea tan urgente y necesario iniciar una campaña de este tipo tenemos a las puertas la campaña de la gripe de la vacunación de la gripe y si en este caso el gobierno no va actuar de manera diferente a como lo ha hecho en otras ocasiones

en la calle en los centros de salud anuncios en los medios de comunicación creemos que la ciudadanía está perfectamente informada otra cosa

es que haya personas que no se quieran vacunar por voluntad propia pero ese como decíamos es otro debate y tampoco creemos que ese planteamiento este hoy en la calle en cuanto a la campaña de la gripe en cuanto a las vacunaciones infantiles bueno pues creemos que el problema está resuelto porque los y las pediatras hacen un seguimiento

por lo tanto como decíamos no creemos que sea un problema a abordar ni con urgencia ni al que haya que destinar más recursos públicos de los que se destinan

eaen barrio jauna zuei esker por lo tanto está muy bien que se preocupen porque la ciudadanía conozca la puesta en marcha de una campaña de vacunación la de la gripe por ejemplo pero estaría mejor aún

pudieran estar administrando esas vacunas de las que ustedes son tan partidarios con absoluta seguridad jurídica sin ralentizar el sistema y sin crear más problemas

sí gracias presidenta y buenas tardes a todos efectivamente antes de comenzar este punto casi tenía dudas si a la altura que me tocaba intervenir a mi

en la filosofía global de lo que el señor barrio planteaba en su iniciativa al menos en el texto original entendía que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo porque la vacunación es uno de los logros más importantes en la historia de la salud pública

que en esto se ha avanzado mucho que hay información que se vacuna y cumplen el calendario de vacunas la mayoría de la población aunque es cierto que en los últimos tiempos

y ellas defienden entendemos que las vacunas es el principal método de prevención y así lo defiende

en su iniciativa principal y desde luego lo compartimos compartimos también la intervención que ha hecho la señora blanco puesto que es verdad que el tema de las vacunas es algo que está en la calle y que preocupa

el calendario de vacunas a los niños y el tema de los mayores sobre todo con el calendario de cumplimiento de las vacunas de la gripe no es justo señor barrio que obvien la situación que ha ocurrido

porque sabemos y todos conocemos que muchos de los datos que tienen que ver con la vacuna sobre todo de las personas mayores en lo que tiene que ver con la gripe

se les ha quitado la posibilidad o la potestad de poner vacunas y usted lo sabe efectivamente pero como dice la señora blanco podremos tener opción de debatirlo lo pueden negar o pueden no negarlo ustedes saben que han venido colectivos a este parlamento a comparecer en la comisión de salud hemos recibido tres grupos parlamentarios en nuestros propios grupos a estos colectivos explicando qué es lo que hacían

para poder seguir dando servicio a la sociedad pero como decía la señora

de debatirlo entiendo que el gobierno hace las campañas quizás

por esto sea negativo pero sí que creo que en esto se ha avanzado las cosas van más bien que regular diría yo en lo que tiene que ver con este tema y luego aquí va a terminar mi intervención puesto que

se va a apoyar por los tres grupos que hemos firmado la enmienda incluso por los grupos de

votos negativos en esta iniciativa pero señor uria yo le escucho y me quedo preocupada preocupada porque usted concretamente es un profesional de la salud por tanto usted debería de ser esa voz que en la comisión de salud nos abra los ojos y la mente

porque yo estar en el parlamento vasco y de escucharle a usted hablar

no lo comparto y me parece que todo no vale no se puede venir aquí a hablar de vacunas y hablar no sé si habrán comprado a aznar a rajoy a zapatero me parece en fin todo no vale en política y desde luego en esto tampoco

gratuitamente lo suelta aquí sin datos sin pruebas sin nada lo suelta y entretanto esto lo une a las vacunas en euskadi que es a lo que hemos venido a hablar nos ha hablado de estado unidos de obama de todos pero usted pertenece a ese colectivo de profesionales de la salud pública vasca esa salud en la que se miran otras comunidades autónomas para crearnos más preocupación

mi grupo parlamentario está muy lejos de poder compartirlo porque creo que el colectivo de profesionales de la salud son profesionales

médicos carteros policías y de todo pero no me parece justo que aquí se empiece a hablar de una generalidad sobre todo viniendo de una personas como usted que profesionalmente se dedica

muchas de las dificultades que tienen los profesionales de la salud para realizar algunas cosas como es el caso de las enfermeras que debieran de estar haciendo y que sin embargo otros se han encargado de romper lo que venía siendo habitual y en esto que yo creía que veníamos a hablar de las vacunas en euskadi porque al final tenemos la competencia para hacerlo

para poder hacer esto cada vez mejor que nuestros niños reciban en el colegio esas vacunas que se les dejaron de poner por el tema de la prescripción de enfermería y que en las residencias de ancianos sean vacunados de la gripe por el tema de la prescripción de enfermería

frases categóricas como en áfrica mueren niños y en europa mueren mayores que los mayores mueran parece que ley de vida toca

claro que la enmienda que usted plantea es otro debate que es lo que le decía el señor barrio

de todo lo que hay detrás de eso que quizá se puede utilizar el dinero público si hay pruebas para ello

utilizarse cada vez mejor para los ciudadanos pero usted no puede hablar de lo que parece que le pasa a obama

por defenderlo parece que fue comprado entre tanto metemos a los investigadores y concluimos que en áfrica mueren niños

porque me parece que como usted sabe el tema de la salud es una de las cosas que más le preocupa a la ciudadanía vasca si atendemos a todas las encuestas que hacemos a los ciudadanos y usted sabe que en esto tiene que incidir y que por eso los presupuestos generales de la comunidad autónoma tienen

a la hora de llevarse dinero público vamos a hacer que eso funcione mejor vamos a decir que nos preocupa que todos seamos vacunados en la mejores garantías y que así podamos ir erradicando determinadas enfermedades

señor uria que no debemos mezclar churras con merinas porque cuando alguien no tiene argumentos concretos para defender algo concreto lo acaba mezclando todo con frases categóricas y casi que eso lo podría hacer yo que no lo hago porque me preparo bien los temas aunque no haya estudiado medicina pero el que no lo puede hacer es usted me parece a mí

su intervención un poco irresponsable desde luego atinando poco a lo concreto hablando mucho de lo general

cómo llegamos para poder justificar que no vamos a apoyar la iniciativa original que todos podemos opinar que se puede mejorar más o menos pero que al final

de la iniciativa por tanto entender que las campañas señor barrio son necesarias seguramente el gobierno podrá incidir para mejorar como está la situación actual de este tema y sobre todo esperar a esa iniciativa que nos anunciado la señora blanco que van a registrar por parte

porque el tema de la prescripción de enfermería también ha influido mucho en lo que tiene que ver con la vacunación en euskadi nada más muchas gracias

una de las medidas sanitarias que más ha mejorado la salud global de la población

de hecho se considera que es una de las intervenciones para los sistemas sanitarios más exitosas y rentables conocidas y ha demostrado ser la de mayor coste beneficio y coste efectividad

con el gasto derivado de padecer la enfermedad y sus consecuencias y es que las enfermedades prevenibles por vacunación suponen un coste alto tanto desde el punto de vista económico como sanitario y social la contribución de las vacunas a la mejora de la salud y de la calidad de vida

su eficacia en la lucha por la prevención de un gran número de enfermedades y para contener brotes epidémicos responde a datos objetivos y no a meras conjeturas en definitiva las vacunas son la herramienta más eficaz y segura con la que contamos hoy en día para la prevención de enfermedades así como un elemento de justicia social y equidad en salud nuestro grupo coincide con estos planteamientos con esta visión

que se haga hincapié en la importancia de poner en valor la necesidad de la vacunación en la prevención de enfermedades por ello entendemos oportuno que el propio parlamento haga suya esta afirmación y en este sentido junto con el grupo socialista hemos consensuado

en cuyo primer apartado precisamente se recoge esta cuestión que acabo de mencionar evidente es por tanto que a día de hoy ya casi nadie duda de que los programas de vacunación se constituyen en uno de los más valiosos activos de la salud pública es cierto sin embargo como ya han manifestado y señalado quienes me han precedido existen corrientes contrarias a la vacunación bien es cierto también que los movimientos antivacunas no son nuevos de hecho yo creo que podemos decir que son casi tan antiguos como las propias vacunas

la preocupación por la seguridad de las vacunas es uno de los principales argumentos que utilizan estos movimientos antivacunas para desaconsejar su uso sin embargo los expertos coinciden claramente en afirmar que los riesgos de las vacunas son siempre inferiores a los beneficios

son mínimos y la cobertura que se alcanza realizando bien la vacunación

aumenta la aparición de muchas enfermedades su seguridad por tanto es alta es muy alta y además son los productos farmacéuticos a los que se les exigen estándares de seguridad más altos

creencias y mitos como ha apuntado anteriormente el señor barrio también

insistiendo en aclarar mucha información contradictoria que hay hoy en día sobre las vacunas lo cierto es que si no se utilizaran las vacunas habría muchos más casos de enfermedad y más fallecimientos por ello la opinión mayoritaria es que sus beneficios superan con creces los riesgos

su preocupación en el tema de la vacunación es permanente en este sentido la labor continua que se ha realizado las últimas décadas en este terreno desde las instituciones vascas

a una gran disminución de la mayoría de los casos de enfermedades inmunoprevenibles infantiles registradas en euskadi los programas de vacunación en euskadi tanto en la edad infantil como en la edad adulta son revisados periódicamente y adaptados debido

siguiendo como no puede ser de otro modo las recomendaciones del consejo asesor de vacunaciones de euskadi consejo integrado por un grupo de profesionales reconocido como expertos en la materia esta necesaria revisión tiene que estar encaminada a garantizar una correcta adecuación de nuestros calendarios de vacunación

de nuestra ciudadanía una revisión que se realiza con el asesoramiento de personas expertas de personas cualificadas con el conocimiento preciso en este ámbito de actuación lo que asegura por tanto la mejor garantía posible en las decisiones que se adopten en cada caso y entendemos que así debe de seguir siendo de hecho así lo hemos recogido en la enmienda que hemos transacionado también en este sentido

se ha llevado a cabo una profunda revisión y actualización del calendario vacunal infantil se han introducido modificaciones de calado en pautas edades y dosis de administración de algunas vacunas infantiles ya incluidas en el calendario

lo que hace que hoy por hoy en euskadi contemos con uno de los calendarios vacunales infantiles de mayor y mejor cobertura a nivel estatal y europeo además estas adaptaciones han derivado en la incorporación de vacunas para la población adulta por lo que euskadi cuenta con prevención de la vacunación en todas las etapas de la vida así mismo desde el departamento de salud y osakidetza en clara consonancia con las recomendaciones de la propia organización mundial de la salud

de que se difunda la importancia de la vacunación para proteger contra las enfermedades a personas de todas las edades por tanto en la necesidad de que se insista en que las personas entiendan y comprendan el valor de las vacunas

desde hace mucho tiempo se viene realizando una importante labor de información en relación a las vacunas porque un buen nivel de información sobre los beneficios que se

en este sentido desde el departamento de salud todos los años se informa en relación al calendario de vacunación y a las novedades que pueda haber en relación a las vacunas

vacunación para la población además es fundamental que a las y los profesionales de nuestro sistema sanitario se les informe sobre la conveniencia de que accedan también a la vacunación porque es evidente

a enfermedades inmunoprevisibles y pueden transmitirlas a las personas vulnerables con las que contactan

importante por tanto incidir en ello como se hace ya desde el servicio de prevención de los centros sanitarios en coordinación con el programa de vigilancia y control de las infecciones

es importante por tanto trabajar en que cada vez haya más profesionales que se vacunan y en esta misma línea nuestro grupo pone claramente en valor la conveniencia

puesto que es fundamental que la sociedad esté adecuadamente informada sobre la conveniencia de la vacunación de manera que con ello se genere un clima adecuado de confianza hacia una herramienta tan eficaz y potente en la prevención de las enfermedades creemos por tanto que es importante que se siga incidiendo en que los programas de vacunación sean asumidos por la sociedad como algo fundamental para la salud pública ya que se han demostrado como una de las medidas más eficaces y beneficiosas así en la enmienda de transacción que hemos acordado también se recoge esta idea

una adecuada información en la que lleva ya muchos años en todo caso nos alegramos de haber conseguido consensuar una enmienda de transacción en estos términos ya que creemos que esto supone un refuerzo al reconcomiendo del valor que a lo largo de su historia

y sigue demostrando que tiene la vacunación en todo caso es importante creo que no desvirtuemos del sentido de lo que queremos destacar y traigamos para ello a colación cuestiones que no son objeto de lo que se está tratando en estos momentos

de otras propuestas de otros momento pero desde luego no creemos que

es fundamental seguir potenciando fomentando y animando a la utilización de las vacunas con las debidas garantías de eficacia y de seguridad eskerrik asko

andrea erantzunen txanda pasatuz barrio jauna bertatik si gracias presentado con brevedad desde el escaño bien

como decía antes también pues tienen que ser objeto de otro análisis no de este no era un debate sobre empresas farmacéuticas o sobre laboratorios no en este debate no la desconfianza de que algunos tienen de las empresas farmacéuticas de los laboratorios

completamente distinta que la seguridad que la necesidad de las vacunas que desde luego estamos tratando de defender con esta iniciativa parlamentaria y en este momento y ante algunas insuficiencias o algún déficit que estamos viendo últimamente en nuestro entorno ese era el propósito si alguna farmacéutica soborna o algún

y también los comités de ética profesionales los códigos de buen gobierno de las instituciones sanitarias y de los gobiernos yo creo que eso es así y además otra de las cuestiones que formaba parte de una crítica bueno que estaba ahí en el discurso en relación con

investigación de vacunas en otras partes del mundo y de enfermedades que desde luego yo creo que la oms la organización mundial de la salud sus agentes fundamentales son las propias empresas

moverse en esa desconfianza cuando siguen siendo muchas de ellas auténticos agentes y pilares básicos del propio sistema de salud pública a nivel internacional

insuficiencias pero desde luego fundamentalmente lo que hay es una labor esencial en relación con la salud pública y

desde luego no para debatir ha hecho algunas críticas en relación con nuestra posición

efectivamente es que la primera capa de la cebolla es la vacunación

la vacunación efectiva el hecho de que eso no se rebaje

el noventa ya es muy grave sería una situación muy grave y eso está pasando en países de nuestro entorno

con los movimientos anti vacunas y en relación con la situación que vemos en profesionales de la sanidad como los nuestros

pero es una referencia de si estamos hablando de promoción de la salud de prevención de las enfermedades

eso es lo que queríamos poner de manifiesto eso será quedarse en la primera capa de la cebolla pues es posible que las siguientes capas de las cebollas sean

que usted hablaba conscientemente porque ese era el aspecto en relación con el procedimiento la prescripción la prescripción es otra cosa el que las vacunas están prescritas y todo el que necesita la vacuna y el que se tiene que vacunar se vacuna el problema no es la prescripción en relación con la enfermería es relación con la vacunación o sea que ese es otro debate que podemos entrar cuando quiera usted ya lo ha anunciado y entraremos pero no es la prescripción el problema de la vacunación señora

estamos haciendo es defender el cumplimiento de la ley en relación con la prescripción en este momento o sea

de la prescripción es muy simple es decir que no sé si buenismo pero ante los riesgos nosotros planteamos esta iniciativa y desde luego un dato malo ya lo he dicho antes

a los crónicos a los enfermos crónicos a las personas mayores y un dato bueno

en cinco años de aplicación de la vacunación en euskadi dos millónes de vacunas ninguna con efectos de salud graves

el noventa y cinco por ciento más o menos del ámbito de la vacunación de las personas sobre todo de los niños en países de nuestro entorno están bajando al noventa y ese umbral es absolutamente peligroso y desde luego las administraciones públicas y el departamento de sanidad hará bien sí incrementa determinados

colegas yo no sé muy bien de que hemos venido a hablar aquí vamos a ver cuando hay problemas que se sitúan en el ámbito de la política los debates son políticos

los políticos quién toma decisiones de poner la vacuna del neumococo la vacuna de la varicela en marcha

entre las comunidades autónomas a ver quién es más rápido a ver quién se legitima más políticamente por poner una vacuna más o una vacuna menos mire natalia rojo

he sido prudente y discreto y no he querido plantear cuestiones de carácter concreto pero si me dice qué datos quiere

una vergüenza al final del gobierno de patxi lópez

en plena campaña electoral hasta tal punto que la junta electoral central

por considerar la junta electoral un acto de propaganda política más cosas los primeros que pusieron la vacuna para el neumococo y para la varicela fueron el gobierno de la comunidad de madrid y el gobierno de la comunidad de galicia y luego hubo una cascada pusieron la vacuna para el neumococo y para la varicela fueron el gobierno de la comunidad de madrid y el gobierno de la comunidad de galicia

jon darpón nuestro consejero al que respeto se contradijo al menos en tres ocasiones con la vacuna del neumococo y con la vacuna de la varicela por qué porque no tenían claros los

de toda vacuna que es relación seguridad eficacia porque no estaban claros por los técnicos pero los políticos la comunidad de madrid fue un ejemplo obvio cuando nadie se puso en marcha se puso a vacunar a su comunidad para más votos entonces si entran estas cuestiones de las vacunas en el ámbito político por qué

que no hablemos de cosas que no tienen que ver con los temas que hemos traído yo acepto la proposición de begoña la parlamentaria compañera y amiga de natalia rojo y de carmelo barrio de hacer un monográfico sobre el tema de las compañías farmacéuticas y sus relaciones éticas con los profesionales sanitarios no solamente acepto estaría encantado

bien en el parlamento de hacer un debate sobre este tema que es muy delicado qué quiere natalia que le diga el nombre de cuántas personas del comité de vacunaciones de euskadi van años tras años a los congresos de epidemiologia de la sociedad

le digo cuántos miembros le digo los nombres qué quiere por qué me pide datos por qué dice que digo cosas generales planteo criterios para analizar un problema que está en el ámbito político y he dicho al principio de mi intervención apoyo la propuesta del carmelo barrio de nuestro parlamentario y amigo apoyo los criterios de crítica contra los antivacunas conozco la historia de los antivacunas hasta tal punto que por los antivacunas cuando el sarampión estaba prácticamente erradicado en estados unidos hubo cuatrocientos mil casos de sarampión en menos de dos años

qué datos quiere natalia rojo tenemos calendarios vacunacionales distintos en las diecisiete comunidades autónomas qué pasa que hay expertos de primera y de segunda en distintas comunidades autónomas son los mismos expertos

y tiene que ver también con la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario es el problema de vacunación de nuestros niños y niñas no

efecto rebaño el efecto rebaño es que los virus y las bacterias circulantes cuando las coberturas como muy bien ha planteado el parlamentario barrio

se neutralizan no tenemos problemas de vacunación tenemos problemas con los que quieren poner vacunas en el mercado que no tienen necesidad epidemiológica

no hay criterios de enfermedad de complicaciones de epidemia ni de número de muertes no hay criterios pero hay que venderlas

que nos confunde a muchos de nosotros no quiero meterme en camisa de once varas pero aquí hemos venido a hablar de política

nos sentamos y hablamos de salud pública cuando quiera y como quiera y si quiere la parlamentaria rojo

demagógicas que he dicho yo estoy a su disposición sabe todo los días en el parlamento y en la comisión de salud eskerrik asko

del partido popular en este caso pero es que claro nosotros sí que le vemos que tiene relación una cosa con la otra porque ustedes lo que aquí solicitan es que se inicie una campaña de vacunación se inicia una campaña de vacunación y luego esas vacunas alguien se las tiene que poner quiero decir una uno no puede ir a la farmacia a comprar

eso ya no se puede seguir haciendo como se venía haciendo no porque gracias a su real decreto gracias a su real decreto ahora deberían de pasar los pacientes

a continuación ponerse la vacuna y después hacer un seguimiento

este debate ciertamente y es que ustedes han sido los que han puesto este sistema patas arriba y ustedes han sido los que han creado aquí un conflicto entre profesionales y es cierto que a veces hablamos de decretos y de reales decretos y claro si cada uno no todo el mundo tiene por qué conocerlo evidentemente pero voy a hacer una comparativa muy fácil para que se entienda usted me está pidiendo que lleve a limpiar mi coche el mío cuando usted me ha pinchado las cuatro ruedas entonces

o cámbiemelas y ya seré yo quien lleve a limpiar el coche y lo dejo

gracias presidenta quién toma las decisiones políticas los políticos

los especialistas y profesionales en cada una de las especialidades de la medicina

yo siendo parlamentaria de este parlamento vasco he ido a foros relacionados con el medioambiente algunos de ámbito internacional con la señora oregi por ejemplo

independientemente de las estrellas del hotel de quién organizaba el congreso y el foro

y hablo de mí porque no puedo hablar de quienes me acompañaban en aquellos foros foro mundial del agua en méxico

ni luego vine a este parlamento y tomé una decisión en la ley del agua vinculada a quién organizaba aquel foro

y usted quiere llevarnos a todos a ese totum revolutum que utiliza su partido aquí y en el ámbito nacional para intentar manchar el prestigio no sé de quién y yo le pregunto

que han acudido a congresos organizados por determinadas empresas farmacéuticas y que después han tomado determinadas decisiones con una ética vamos a ponerla en duda según su propia afirmación les conoce

si los conoce vaya a los tribunales y si no usted es un irresponsable eso es lo que le digo y no vale decir políticos comprados quién por quién y cuándo a los tribunales

y manchar el nombre de colectivos en general porque a ustedes se les han olvidado que cuando hablan de políticos en general intentando manchar el nombre del colectivo es que ustedes

qué es eso de que hay políticos comprados qué datos quiero reales nombres y apellidos y lo que le pido después es que dado que usted está tan informado vaya a los tribunales porque si eso es así

pero no puede venir aquí y parlamentaria rojo qué datos quiere qué quiere que le diga quiero seriedad

y quiero que cuando usted haga política que por supuesto es obligación porque para eso está siendo un partido de la oposición haga política de verdad

es que hay un dos por ciento de niños que no se vacunan y responde a esto o por favor investigue por qué no se vacunan

eso es lo que le pido y luego dice que mire nunca se lo iba a haber dicho porque tampoco me parece bien y usted habla porque cuando acabó el gobierno del señor lópez

no se puede confundir lo que era la vacuna con el acto en el que se iba a presentar churras con merinas otra vez

en aquella época colaboraba de forma muy estrecha con el grupo de salud del partido socialista de euskadi con bengoa a la cabeza parece que tan mal no le parecía

digo yo se me ocurre y no tiene nada que ver lo que se entendía el gobierno

con el señor bengoa como consejero respecto a una vacuna concreta con el acto en el que iba a presentar la vacuna

pues mire aquí venimos a hacer política efectivamente pero no de cualquier manera ni a cualquier precio ni tocándolo todo ni creando alarmas sociales y le vuelvo a decir lo mismo estamos en un momento político bastante serio en todo en general

tuviéramos mesura responsabilidad y

tuviéramos argumentos datos y un poquito de ideología a ver si recuperamos la ética que había antes

porque yo soy muy joven pero llevo tiempo aquí y se puede comparar y señor uria usted es médico

a hablar de las vacunas defendiendo a su colectivo de profesionales y decir que efectivamente

señor barrio que no es como usted lo cuenta ha hecho a los médicos

las enfermeras se les hayan quitado competencias y tengamos el sistema de vacunas como lo tenemos es lo que usted tenía en mi opinión

y no acepto ni que los políticos están comprados en general

los que van a los congresos toman decisiones en función de quién les paga el hotel de cinco estrellas

pero desde luego los partidos políticos que tenemos historia e ideología y hablo por el mío

nada hemos venido a hablar de la sanidad y de las vacunas en euskadi

salud pública pero cómo que no de la política de la salud pública o de la política en general

creo que usted no ha entendido qué hace sentado en ese escaño eskerrik asko

otalora anderea bertatik otalora

sí sí

en un tema en el que bueno veía que estábamos todos de acuerdo en la importancia y el valor que tiene las vacunas lo que pasa que la verdad es que viendo

ha puesto sobre la mesa cuestiones diversas simplemente sí que quiero poner de manifiesto en estos casos en los que hemos traído una cuestión en la que insisto creo que estamos todos de acuerdo

eso dar importancia entonces bueno que me parece que es una pena sin más gracias eskerrik asko

lagundu dezala eremu horietan krisi hori dela eta el parlamento vasco insta a la unión europea a liberar liderar barkatu el total de la asignación económica correspondiente aprobada para los campos de refugiados saharauis para el año dos mil diecisiete

la recientemente aprobada declaración de vitoria gasteiz del pasado treinta de septiembre del dos mil diecisiete dentro de los trabajos de la vigésimo primera conferencia de intergrupos

a que aumente la cooperación y la ayuda humanitaria a la población saharaui

al constatar como preocupación la reducción de las aportaciones de la agencia española de cooperación en los últimos años halaber eskatzen du